por enésima vez el asunto relacionado con el registro de los centros especiales de empleo más de media legislatura hablando del mismo tema

unas cuentas horas de discursos de intervenciones de argumentaciones la verdad es que no es agradable no es agradable

y el gobierno parece que a pesar de que es muy pegadiza la melodía tan pegadiza que todas las comunidades autónomas

sus correspondientes registros este gobierno se ha ido demorando con argumentos de lo más diverso ni siquiera es capaz de tararearla la canción eso sí nos cuenta que pajaritos por aquí pajaritos por allá porque la moción viene de una interpelación

nos decía exactamente al final en su réplica

el hecho de que no exista un registro no hay que asimilarlo automáticamente a que no haya más centros especiales de empleo

pero puede haber más centros especiales de empleo aunque no estén registrados o aunque ese registro en concreto el nuestro todavía no se haya puesto en marcha pero para que no haya duda me veo en la necesidad de aclararle que los centros especiales de empleo

que se encuentren inscritos al registro de centros especiales de empleo y esto sí es importante vaya resulta que hace como año y pico nos mandó el gobierno a esta cámara una propuesta

de borrador de decreto y decía en la justificación

que la creación de los mencionados centros exigirá su calificación e inscripción en el registro de centros de las administraciones que crearán dentro del ámbito de sus competencias

señor consejero señor lehendakari el reglamento la propia ley de economía social toda la normativa concordante del decreto de transferencias todo habla de que la habilitación para los registros especiales de empleo para los centros especiales de empleo es la calificación e inscripción en el registro esto es

imperativo no puede ser de otra manera pero el gobierno como vemos en la respuesta nos dice que no

esta medida y va a tener que crear ese dichoso registro pero es que para entonces

para los restos que el gobierno tuvo que hacer una cosa de estas que en fin que forma parte

que como tantas otras pues en fin se demora más de lo necesario y es por esta razón yo no me voy a extender más ha habido pronunciamientos en este sentido y volvemos a reclamar a esta cámara que se vuelva a pronunciar antes

y así dice la parte propositiva se ponga en marcha por fin el registro de centros especiales de empleo permitiendo de esta forma dar cumplimiento a las políticas

con discapacidad el gobierno y el partido que lo sustenta tiene una posición política consolidada pero eso no le debe de permitir ver la vida pasar tiene que

el tiempo de gobierno no es para recrearse en esa sólida posición con un futuro venturoso sino que es necesario utilizarlo para llevar adelante

en el día de hoy y esta es una medida que no tiene para nada ningún trabajo todos los decretos de las autonomías son de formulario varían en alguna cuestión en algún concepto

más de un año y medio no lo ha convertido en un decreto y no es verdad señor consejero que se pueda operar sin esa calificación e inscripción porque todas las cuestiones atinentes

van asociadas al hecho de la correspondiente calificación e inscripción por lo tanto me va a sobrar

pedimos a esta cámara que se vuelva a pronunciar sobre esta cuestión y de su aprobación exigiendo al gobierno que antes de que acabe la legislatura que toca su fin cree de una dichosa vez ese registro no es un empeño caprichoso sino que hay demandas concretas en la interpelación también planteamos

referidas a los informes que hablan de variaciones en el número de centros especiales de empleo bueno eso más o menos quedó aclarado lo que queremos señor consejero no haya que andar digamos con circunloquios ni con evasivas ni con respuestas contradictorias como la que vemos aquí queremos que efectivamente esta sea una decisión que dé cumplimiento a ese acervo competencial y ponga en marcha

el dichoso registro para los centros especiales de empleo nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna zuzenketak aurkeztu

gracias señora presidenta buenos días a todos

en este parlamento a una le parece estar viviendo el día de la marmota verdad una y otra vez los mismos debates

que también sino fundamentalmente porque esto que es un asunto acordado y debatido en esta cámara

y lo que se acuerda en este parlamento pues al final queda en el limbo porque como ha dicho el señor itxaso

la necesidad de la creación del registro de los centros especiales de empleo pero es que hace un año estábamos debatiendo de esto también y hace dos

el origen de esta iniciativa de esta concreta iniciativa como ha señalado el señor itxaso es que el observatorio vasco economía social indica un informe que ha habido un incremento de los centros especiales de empleo

es cierto que para la creación de esos nuevos centros sería necesaria la obtención de la calificación por parte de la administración y su posterior inscripción en ese registro de centros

y lo que ocurre en nuestro caso en euskadi es que dicho registro no existe y las razones que se dieron el otro día

es que el gobierno vasco tiene previsto elaborar de una normativa que regule la creación y funcionamiento un marco más amplio y después de esto aprobar el decreto que según él no es cosa fácil ni que lleve poco tiempo y desde luego eso nos ha quedado claro señor toña que poco tiempo no lleva y también nos dijo que

más general la verdad es que una pensaba

que los vascos estamos en la vanguardia que éramos de los más listos

pero si tenemos que juzgar por las actuaciones de nuestro gobierno en este y en otros asuntos pues vemos que no que no somos los más listos de la clase porque la verdad es que

señor consejero pero es que otras comunidades como ha dicho el señor itxaso lo tienen desde hace tiempo desde hace bastante tiempo luego por lo visto

decreto las han sabido salvar muchísimo mejor que nosotros y nosotros mientras tanto no tenemos registro y lo que hacemos es seguir debatiendo sobre ese registro de los centros especiales de empleo y el decreto que tiene que regularlo

que este decreto la competencia se traspasa a lanbide en el año dos mil diez y en teoría

decía que el momento del decreto estaba cerca y yo

pero si no se lo voy a decir igualmente es que o una de dos o no vio el capítulo de barrio sesamo de cerca y lejos

el resto porque desde octubre aquí y seguimos sin decreto pues cerca cerca no es porque llevamos seis años para elaborar el decreto y por si me hablan los representantes del partido nacionalista vasco del gobierno anterior pues diré que el gobierno anterior es verdad que lo pudo realizar pero es que ustedes llevan ya más tiempo que el gobierno anterior llevan casi cuatro años estamos en junio del dos mil dieciséis y el decreto

se han tirado toda una legislatura y en toda una legislatura hemos sido incapaces de sacar este decreto

del retraso que pudiera producirse en los trámites legislativos pendientes porque es que solicitábamos muchas comparecencias y ustedes porque por lo que contó el señor toña de a quién se va a consultar este decreto pues se ha consultado hasta al maestro armero

si la participación de sindicatos de representantes empresariales de asociaciones del tercer sector

lo que ocurre es que yo creo que se pueden hacer en menos tiempo porque claro a todas esas aportaciones y todas esas consultas después están los informes precedentes y en el último es el de la oce que parece que el órgano de control económico que es uno de los que está pendiente

tanto tiempo es necesario para elaborar esos informes y lo que tenemos que decir a este respecto es que lo hemos dicho otras veces que se ha debatido más importante que tener las competencias es saber ejercer las competencias cada vez que alguien sube a esta tribuna alguien del partido nacionalista vasco a presentar una iniciativa o a presentar una enmienda

cojan ustedes la referencia hidrográfica que más les guste reclaman más competencias y un nuevo estatus

como no podía ser de otra manera pero en este parlamento los vascos en lo que estamos

que sí tienen y que no las aplican bien porque no no lo están haciendo bien y una clara muestra de ello es este

pero hay más porque cuando se trata de exigir a este gobierno es el primero pero cuando se trata de hacer en el furgón de cola y no hay más que ver la ingente producción legislativa que ha remitido a este parlamento este gobierno no hay más que ver el fracaso de las políticas activas de empleo con el porcentaje de intermediación que tiene no hay más que ver cómo está lanbide

no hay más que ver como decía este asunto que es un botón de muestra que llevamos años solicitándolo en esta cámara y todavía

y es que cómo vamos a pretender que funcione bien lanbide si un decreto que otras comunidades tienen como he dicho en otra ocasión desde el siglo pasado nosotros todavía

ayer estuvimos hablando de lo importante que es el empleo de las personas

de integración el empleo protegido y el empleo ordinario del papel que realizan los centros especiales de empleo en la consecución de esos objetivos tanto para conseguir ese empleo protegido como para realizar el tránsito hacia el empleo ordinario pero para eso

existan nuevos centros especiales de empleo que no se pueden crear si no existe el registro y al final es la pescadilla

entre todos conseguimos que el parto de los montes por fin vea la luz eskerrik asko llanos andrea

solamente tres precisiones importantes señor itxaso no es necesario el registro de los centros especiales de empleo para que dichos centros operen a pesar de las múltiples ocasiones a las que usted hizo referencia

respecto a dicha necesidad segundo los datos que usted mencionaba el día de la interpelación son los del observatorio vasco de economía social y no es que el gobierno vasco o el grupo que lo sustenta no le demos valor a la objetividad de los datos de sus informes todo lo contrario lo que el consejero explicó

se refieren única y exclusivamente a los centros especiales de empleo dentro de la economía social existiendo centros especiales de empleo en muchos otros ámbitos y tercera precisión se quiso aprovechar tal y como le explicó el consejero el momento de desarrollo de la normativa

realizar un estudio integral estudio que muestre una fotografía actualizada del empleo de las personas con discapacidad posibilidades y oportunidades de este colectivo y compartimos con el gobierno esta posición más ambiciosa que la recogida

respecto a la creación del registro única y exclusivamente insistimos en que dicho decreto se halla en fase de tramitación de los informes preceptivos de la administración en concreto a día de hoy falta el informe de legalidad y el del ces el del consejo económico y social

y tal y como ustedes solicitan será cuanto antes para finalizar queremos poner en valor la labor de acompañamiento del tercer sector que en este ámbito también

y decir respecto a las intervenciones de los portavoces anteriores

de la legislatura para hablar de incumplimientos de tardanza del gobierno

en el estado como la del estatuto que todavía no ha sido cumplida

esto yo me quiero quedar con lo positivo y la iniciativa de hoy era para instar al gobierno para que traiga cuanto antes

regulador del registro de los centros especiales de empleo que como quedó claro el día la interpelación y como queda claro hoy está

aprobado por consejo de gobierno antes de que finalice la legislatura por lo tanto

está bien que la campaña electoral empieza hoy a las doce y haya que aprovechar para dar por aquí y por allí pero

en el punto que nos corresponde y dicho decreto vendrá a esta cámara antes de que finalice esta legislatura besterik ez mila esker eskerrik asko arregi

pues no la verdad es que la razón de traer este asunto una vez más no ha sido desde luego la campaña electoral porque este tema lo hemos tratado muchas veces sino ha sido justamente la

contradicción de bulto que hay entre lo que dijo el consejero que he leído

bueno yo le voy a leer el artículo cinco de la ley cinco barra dos mil once de economía social donde dice que forman parte de la economía social las cooperativas mutualidades etcétera empresas de inserción los centros especiales de empleo las cofradías es decir por definición legal

forman parte todos ellos de la economía social pero para que puedan ser considerados así se exige su calificación y la calificación solo la da el registro

se produce la inscripción eso está también como digo en el real decreto dos mil doscientos setenta y tres barra ochenta y cinco del reglamento de centros especiales de empleo que desarrolla

es que bien nosotros entendemos que en esta materia igual sería deseable mayores cotas de autogobierno no lo discuto pero es que en este punto la legislación laboral nosotros no tenemos competencia ni siquiera en desarrollo solo de ejecución de ejecución y es que vemos que no se ejecuta no se ejecuta y

porque si la ley establece que es un requisito imprescindible y es imperativo nos parece en fin hablar

para poder operar porque sin esa calificación sin esa calificación se podrán llamar de cualquier manera menos centros especiales de empleo porque la ley

y cuál es el trámite que se exige para que sean así considerados por lo tanto no es un capricho no es fruto de campaña ni es nada por el estilo entendemos que

que surge además de alguna explicación no conocida porque esta demora no se puede explicar solo en la ineptitud no hay tanta como para

que son los que yo he reproducido son totalmente contradictorios y yo no me creo que el gobierno pueda incurrir en esos errores de bulto salvo que tenga realmente alguna intención o alguna motivación que por las razones que sea pues no es explicitable pero nosotros que tenemos que hablar en fin

una vez más que se cree ese dichoso registro para que al menos al menos podamos acabar con esta polémica de una vez por todas eskerrik asko itxaso

gracias de nuevo señora presidenta bien lo primero

que evidentemente la labor que están haciendo los centros especiales de empleo que ya existen es una labor importante y buena pero eso no quiere decir y no debe ser impedimento

yo creo que en esto cuanto más mejor cuanto más mejor se dice es verdad como dice el señor itxaso que existe una ley que requiere como requisito para poder es operar como centro especial de empleo el estar inscrito en ese registro desde el gobierno vasco se dice que no

insto públicamente a todas esas iniciativas que hay a que contacten con lanbide para empezar a operar inmediatamente

esa inscripción si no es necesario pues entonces pueden operar directamente pueden acudir a ayudas exactamente igual que los centros

insto porque además así parece que ha sido reconocido por el gobierno por el grupo que apoya al gobierno que esas iniciativas pueden operar

para empezar ya porque en teoría la inscripción en el registro no es necesaria y luego yo es que no sé qué

razones ocultas puede haber para no querer crear el registro entonces como no

para no crear el registro solo lo puedo achacar a una cosa y es a la lentitud de este gobierno vasco a la ineptitud de este gobierno vasco porque no entiendo que algo que en otras comunidades autónomas se ha hecho mucho más rápidamente aquí no se haya podido hacer porque es que la primera interpelación que se hizo en este asunto fue el señor aburto que lleva un año de alcalde en bilbao

esto que lo tenía que cumplir luego se le hizo otra interpelación al señor toña seguimos sin decreto y la hace quince días se hizo otra interpelación y el decreto antes era cerca ahora es cuanto antes

del barrio sesamo y también en cuanto antes tenemos los mismos conceptos

dos informes y decía que es que estamos en campaña electoral que esto se saca o que las críticas se hacen por campaña electoral no las críticas salen solas lo que es electoralista es la medida que la diputación de bizkaia anunció ayer

que no se va a poner en marcha hasta el año que viene pero se anuncia justo un día antes de que comienza la campaña electoral

dice que aprovechamos para hacer las críticas si usted misma

acaba de dejar patente que cada vez que un nacionalista

es para reclamar competencias no transferidas pero mire se lo dije la otra vez ustedes pedían de boquilla

porque no la querían aceptar la aceptaron se la encontraron ya aceptada por el gobierno del partido socialista y realmente han mejorado las políticas activas de empleo reguladas por ustedes

cuáles son las tasas de intermediación que tiene lanbide y cómo funciona lanbide se lo he dicho hasta el propio viceconsejero reconoce que no es un instrumento

luego como le digo ustedes están en todo el derecho de reclamar pero el resto estamos en todo el derecho de exigir que lo importante será tener la competencia pero

es saber ejercerla y ustedes estos cuatro años han sido los campeones de la ineficacia en la gestión de las competencias que tienen conferidas nada más muchas gracias

queremos reivindicar la buena labor que hacen los centros especiales de empleo

no hay registro por lo tanto están funcionando por lo tanto volvemos a insistir en que no es necesaria la existencia de dicho registro pero no se preocupe señor itxaso que

aprobado en consejo de gobierno antes de que finalice esta legislatura y de eso es de lo que se trata la iniciativa de hoy

yo no he dicho que se traiga este tema aquí en campaña electoral señora llanos lo que he dicho es que usted está aprovechando que hoy a las doce empieza la campaña electoral para hablar de la ineficacia de este gobierno de la parálisis etcétera el runrún y el mantra que vienen repitiendo en esta última temporada y que ahora como se acerca la campaña electoral hoy pues qué mejor que aprovechar que si lanbide que si la intermediación de lanbide

la intermediación de lanbide está muy por encima de la intermediación que realizan el resto de servicios públicos de empleo del estado y a niveles europeos

cuando la competencia aquí llegó el dos mil diez en seis años ha conseguido estar muy por encima de la media del estado

y no se preocupe que en todo aquello que tenemos competencias las ejercitamos mucho mejor que en el resto del estado ahí está osakidetza

se seguirá mejorando y será mucho mejor que en el estado porque está demostrado que cuando las competencias ejercitamos aquí las cosas funcionan muchísimo mejor que en el resto del estado

ese registro de los centros especiales de empleo va a ser traído antes de que finalice la legislatura que es de lo que se trata la iniciativa de hoy besterik ez mila esker

cuando supimos que este gobierno había cerrado el año con doscientos setenta y siete millónes de euros menos de ingresos por recaudación a pesar de que habían hecho una revisión en octubre sobre las previsiones de cierre ya preguntamos al lehendakari

de la política fiscal la respuesta en este caso del consejero gatzagaetxebarria fue básicamente que había que darle tiempo la reforma fiscal que el pnv y el partido socialista habían firmado en el año dos mil trece martxoan jada

zerga bilketa ez betetzearen aurrean ya en marzo instamos a este gobierno a que explicara qué medidas

ante la más que presumible reducción de ingresos del ejercicio dos mil dieciséis

pero una vez más el consejero gatzagaetxebarria como no podía ser de otra manera se limitó a repetir los argumentos que ya habían utilizado para explicar

y a decirnos que esperáramos que todavía quedaba mucho año por delante gaur gaur ekainean gaude jada ia urte erdia pasatu da

ematen digute en resumidas cuentas

que previeron para el ejercicio dos mil dieciséis en cuatro meses no solo es que no hayan incrementado sino que llevan un decrecimiento de once millónes de euros

curioso que dos instituciones gobernadas por el mismo partido dos instituciones que vienen utilizando la misma argumentación para tratar de explicar el descalabro en la recaudación fiscal en cambio a la hora de enfrentarse al problema opten por posiciones distintas sí ya sé que me van a decir

el principio de prudencia pero señorías eso se da por descontado en la gestión económica el tema es que mientras uno avisando de que habrá obras que se quedarán en el tintero otro en este caso el gobierno vasco

de esperar de darle tiempo a la reforma fiscal

quizá sea eso lo que está pasando la verdad es que esto viene siendo una máxima de este gobierno esperar llevan toda la legislatura esperando y ya se lo he dicho

de estos cuatro años pero es que cada día que pasa cada día es más evidente que siguen esperando

qué va a hacer este gobierno qué va a hacer este gobierno ante la más que evidente reducción de ingresos por tributos desde los grupos que sustentan la política económica del gobierno el partido nacionalista vasco el partido socialista ya sé lo que me van a decir

en este hemiciclo el lehendakari no vamos a recortar los pilares del modelo vasco de protección social sanidad y lucha contra la exclusión vamos a mantener la calidad en los servicios públicos esenciales para la ciudadanía miren como frase de cabecera está muy bien pero hasta ahí no dura más dejando a un lado que desde eh bildu estamos estos presupuestos como todos los de esta legislatura sí llevan recortes en las políticas básicas del bienestar qué va a hacer este gobierno retrasar inversiones ralentizar gastos

y junto a la política fiscal no podemos olvidarnos de la política de endeudamiento

es evidente que la visión sobre el uso de estas herramientas que tiene el gobierno y los dos partidos que sustentan su política económica

a la que defendemos desde euskal herria bildu escudándose en cumplir con las normas de gobernanza europeas han convertido en tótem de su gestión

que responden a problemas del estado y no responden a la realidad socioeconómica de araba

ahora ahí están otra vez a la espera siempre a la espera esperando a ver qué hace el gobierno de madrid con la prórroga de plazo para el cumplimiento del déficit con la

que le conceden desde europa una vez más esperando a ver si sale el conejo de la chistera baina hori ez da

discrepamos con bildu digo para que quede claro porque también coincidimos en muchas de las cosas que se han dicho pero para que quede claro que discrepamos con bildu

en el déficit bildu plantea que es bueno y por eso no habría que incumplir

porque consideran que tener más déficit es bueno es decir endeudarnos más es bueno y nosotros pensamos todo lo contrario nosotros preferiríamos no deber nada a nadie preferiríamos tener superávit y cuando llegan las épocas de vacas flacas

cosa que el gobierno vasco en otras épocas hacía y digo en otras épocas

en el consejo vasco de finanzas cuando se hacían las previsiones de recaudación ellos lo llamaban criterio prudente básicamente el partido nacionalista vasco

y entonces el gobierno vasco contaba en el último trimestre del año con unos digamos cien

para gastar o invertir en ese ejercicio presupuestario al margen del control del parlamento sin embargo parece que

el pnv se equivoca siempre en el consejo vasco de finanzas lo cual a mí me sorprende porque antes no se equivocaba nunca y siendo los mismos parece

es el enfoque que se le da a esas previsiones y así si antes el enfoque era de rigor o máximo rigor para no cometer excesos presupuestarios ahora parece que estamos en la situación contraria y luego lo compensamos

cosa que hasta esta legislatura no habíamos oído en este parlamento

que yo he estado el gobierno vasco pnv las diputaciones forales

son del partido nacionalista vasco curiosamente cuando había algunas más distintas pues parece que se acertaba más pero los técnicos hasta donde yo

la legislatura pasada parece que se acertaba más cuando había tres diputaciones distintas

no ocurrían estas cosas pero de qué podemos hablar podemos hablar de un fracaso que es un pacto partido nacionalista vasco partido socialista

en base a la cual se hizo el cuento de la lechera de planes que se iban a financiar

se iban a financiar con los mayores ingresos que se iban a obtener de esa reforma fiscal

financiar con los mayores ingresos que íbamos a conseguir

con esos dos yo solo sé que en el año dos mil quince

esa reforma fiscal no se llegaron a recaudar se recaudaron

que en el dos mil siete mil millónes de euros menos que la previsión para este año

de euros es decir setecientos millónes menos la previsión setecientos menos que en el dos mil siete pese a la subida de impuestos y que sea a todo lo que se ha incrementado la lucha contra el fraude fiscal etcétera etcétera etcétera y ahora que sabemos pues que

es más hasta la fecha estamos en negativos en menos uno por ciento

y el año pasado ocurrió lo mismo y como casualmente acaba de llegar la liquidación la previsión de cierre del gobierno a treinta y uno de diciembre de dos mil quince pues tenemos los datos

para el gobierno vasco pues como se ha dicho más o menos seiscientos ochenta millónes de euros de los previstos en el presupuesto de los previstos en el presupuesto y dónde

de las diputaciones porque no se ha alcanzado la recaudación prevista doscientos veinte millónes de la inejecución

del tramo del gobierno vasco del tramo guipuzcoano lo cual no deja de tener su gracia cuando se han pasado ustedes cuatro años aquí dándonos la matraca de que el gobierno de mariano rajoy

doscientos veinte millónes de euros sin ejecutar según su presupuesto y otra partida interesante

no vamos a recibir de la unión europea y que teníamos previsto recibir casualmente en qué se ha traducido esto y digo casualmente porque no es casual en qué se ha traducido pues en que la previsión de inversiones del gobierno vasco

que era de mil cien millónes de euros pues ha quedado en setecientos millónes

más de cuatrocientos millónes de euros y en qué ha dejado de invertir el gobierno vasco esos cuatrocientos millónes de euros pues básicamente

en dos departamentos verdad en medioambiente menos doscientos setenta millónes

hombre y curiosamente menos cincuenta millónes en educación pero esto es en las obras que había previsto hacer en las escuelas de primaria y secundaria es decir en las inversiones esto es lo que se ha dejado de invertir

en qué se ha gastado o qué es lo que no se ha hecho hay un programita que lo puede mirar se llama a fondo de innovación programa cincuenta y cuatro barra catorce

veintidós millónes ejecutado diez ejecutado diez para pagar de los años anteriores porque en la que tenía que haber salido este año el emaitek dos mil quince de doce millónes cero cero

y así podríamos hablar pues del programa extraordinario de concesión de avales públicos para financiación de empresas que de ochenta y dos millónes pasa a sesenta y dos

hablado de los encargos a eusko trenbidea

del fondo de innovación que se queda en la mitad desarrollo industrial y apoyo a emprendedores de setenta y seis millónes a cuarenta y uno millónes

que este gobierno durante el dos mil quince porque la no ejecución que ha hecho ha sido básicamente esta

hubiera invertido de verdad este dinero hubiera ejecutado esas partidas

en crecimiento de empleo en qué se iba en cuánto se podía traducir yo creo que nos hubiera ido mucho mejor yo creo que hubiera habido

desde el principio desde hace tres años que este gobierno no aporta nada a la creación de empleo vamos a remolque de lo que se va haciendo en españa de las medidas que se toman en españa españa sube al cero coma ocho pues nosotros subimos al cero coma siete o al cero coma ocho

por qué porque nosotros no aportamos nada dónde está el diferencial del país vasco con españa en crecimiento del pib o en el empleo nada la misma curva

literal cuál ha sido la aportación de este gobierno vasco

pues tenemos que decir lo que lamentablemente cero poco o nada ha sido un fracaso absoluto en lo que a la gente le importa que es la creación de empleo estable y de calidad

lo que estamos pidiendo es que en este año que estamos viendo que va a pasar lo mismo que el año pasado el gobierno vasco no haga lo mismo y sí apoye y sí apoye esas partidas esas inversiones cuando hablamos aquí de los parados de larga duración que generalmente son que ya no son de más de cincuenta años que hay muchos

imposible recolocarlos en ningún otro sitio pero si todas las inversiones donde podría trabajar esa gente se paralizan disminuyen o se quitan pues es evidente que no estamos ayudando en nada a ello

sí muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos aunque el ambiente esté algo

y quizás muchos de nosotros y sobre todo de ustedes estén ya pensando en las próximas elecciones generales

relevancia y que merecería una respuesta contundente de la oposición de este parlamento al gobierno vasco que padecemos

efectivamente apenas han intervenido dos personas de momento en este debate pero ya se han planteado muchos asuntos muy relevantes se han dicho muchas cosas muy importantes casi todas ciertas y creo que lo único que faltaría sería firmar una enmienda de transacción que diga claramente que

gobierno en relación a todo lo que tiene que ver conlos presupuestos con las inejecuciones presupuestarias con las estimaciones de ingresos es algo muy censurable y espero que podamos llegar a esa transaccional para decirlo claramente y que este debate muy importante no pase desapercibido porque encontramos ante un cúmulo de mentiras y de falsedades presupuestos que se elaboran se debaten en esta cámara se aprueban al menos por dos de los grupos que tenemos representación o que tienen representación

no se cumplen presupuestos que se presentan se enmiendan se trabajan y luego vemos como efectivamente no se cumplen estimaciones presupuestarias falsas o falseadas estimaciones de ingresos

o que van a incumplirse inejecuciones presupuestarias que suponen recortes en ámbitos de extraordinaria importancia para el crecimiento económico la creación de empleo y el incremento posterior de ingresos fiscales lo cual implicaría el fortalecimiento del estado

por lo tanto son asuntos muy relevantes posiblemente lo más importante que tenemos entre manos qué hacemos con nuestro dinero público cómo conseguimos tener

que obtenemos por eso digo que yo espero que este gobierno después de este debate en fin reciba el varapalo político que creo que merece la semana pasada yo al lehendakari

le preguntaba sobre lo que estamos debatiendo sobre el desplome de la recaudación fiscal en euskadi y yo decía que la recaudación de impuestos del primer cuatrimestre tiene signo negativo aunque los ingresos de gipuzkoa han crecido el ocho coma dos por ciento de enero a abril

con estos datos se antoja imposible cumplir las estimaciones presupuestarias de ingresos que se establecieron en un aumento del siete por ciento por lo que tanto las diputaciones forales

decía que más allá de las erróneas estimaciones realizadas en su momento y las responsabilidades políticas que por ellas deban exigirse es momento de que en este caso el lehendakari explique en sede parlamentaria las medidas que va a tomar para cuadrar los presupuestos y cuáles van a ser las partidas que van a reducirse

que se mantengan al margen de cualquier tipo de recorte aquellas partidas que implican servicios públicos atención a las personas más vulnerables gasto social

ni otros gobiernos cuyas decisiones nos afectan han hecho en el pasado por tanto yo concluía que el lehendakari debe cuanto antes aclararlo y esa es la pregunta que un servido le hizo al lehendakari cuáles son las decisiones que el gobierno vasco va a tomar

del año y lógicamente teniendo en cuenta lo que puede ocurrir de aquí al treinta y uno de diciembre el lehendakari contestaba de manera

días atrás y que venía recogido en un medio de comunicación se trata según el lehendakari de invertir con rigor en lo importante

en todas las circunstancias hubiera o no bajón recaudatorio es decir venía a reconocer que esto no se ha hecho en el pasado

se trata de invertir con rigor en lo importante yo creo que habría que analizar varias cosas qué es lo que ha pasado

el partido nacionalista vasco el partido socialista de euskadi que aprobó estos presupuestos

en qué se basó para realizar esta estimación de ingresos tanto el consejo vasco de finanzas como los grupos políticos que apoyaron finalmente el proyecto de presupuestos

exigir responsabilidades políticas para todos esos dirigentes políticos que fallaron en sus estimaciones bien porque no acertaron bien porque sabían que lo que planteaban era imposible de cumplir y en ese sentido ciertamente y recientemente un catedrático de hacienda argumentaba y explicaba que ningún dato sustentaba aumentar la recaudación el siete por ciento pero es algo que dentro del consejo vasco de finanzas y aplaudido por otros grupos políticos y especialmente por el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi se dio por hecho esto no se cumple y ahora por lo tanto toca decidir qué es lo que se va a hacer qué decisiones van a tomarse a la vista de los datos que ya tenemos y al más que previsible incumplimiento del presupuesto de ingresos y de la recaudación decisiones que deberán tomarse

plazo y decisiones que deberán tomarse para el medio

en nuestra enmienda de totalidad podemos compartir lo que plantea eh bildu en su moción original también lo que plantean otros grupos

ampliar quizás las cosas que deberían hacerse así como las responsabilidades políticas que deben exigirse y así lo que nosotros planteamos es que este parlamento exija al gobierno vasco

y por lo tanto salvaguarde el estado del bienestar la educación la sanidad las prestaciones sociales las inversiones productivas

y todas aquellas partidas presupuestarias indispensables para lograr más bienestar más desarrollo económico más justicia social y más creación de empleo digno

que impulse todas las reformas y medidas que sean necesarias para reducir el gasto improductivo que sigue existiendo en euskadi consecuencia de su sobredimensionado entramado institucional de la de organismos públicos y semipúblicos cuya existencia no está justificada aquellos gastos innecesarios que responden a intereses exclusivamente sectarios o partidarios proponemos también que este parlamento inste al gobierno

a multiplicar esfuerzos en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal lacra que perjudica gravemente

y las indispensables políticas sociales y finalmente proponemos que este parlamento inste también al consejo vasco de finanzas a calcular y justificar adecuadamente

que anualmente realiza yo por la experiencia que tengo en este parlamento nunca acierta el consejo vasco de finanzas a los ingresos presupuestarios del ejercicio siguiente es algo que hemos reiterado prácticamente siempre en todos los debates sobre presupuestos nunca acierta siempre plantea más ingresos de los que posteriormente se concretan y esto es extraordinariamente grave porque en fin debatimos unos presupuestos pensando que van a ser esos los que finalmente se apliquen

todos los años que finalmente no son esos presupuestos los que se aplican sino que además contienen nuevos recortes ajustes o inejecuciones presupuestarias en fin por lo tanto son muchas cosas

responsables políticos el consejo vasco de finanzas

vasco el partido socialista de euskadi que aprobó estos presupuestos y además hay que exigir al gobierno vasco que tome una serie de medidas de aquí en adelante para que no se produzca ningún tipo de recorte en todo lo que tiene que ver el estado del bienestar las inversiones productivas

que crea empleo y que por lo tanto va a crear en el futuro más o menos inmediato nuevos ingresos esto es lo que creo que deberíamos compartir una mayoría de grupos lo dicho creo que es un asunto

relevancia me gustaría que no pasara desapercibido y que el gobierno vasco

una respuesta contundente por parte de los grupos de la oposición por el mal trabajo realizado durante los últimos meses gracias

señorías yo afirmo que el primer problema que tiene en estos momentos la política vasca que tiene este parlamento que tiene el gobierno vasco que tienen las tres diputaciones forales que tienen los ayuntamientos y que toda la ciudadanía representada en estas instituciones es la recaudación el primer problema

es la evolución de la recaudación el problema está en si utilizamos las instituciones entre ellas hoy esta para concluir que

a la baja de la recaudación es irreversible y por lo tanto a lo que nos podemos adecuar en la actividad política es exclusivamente a la crítica o si consideramos que es reversible que debe ser reversible

para hacer que sea reversible y el partido socialista en su estilo de compromiso político con la ciudadanía

las instituciones funcionen y las políticas públicas se hagan con un carácter social con un carácter de igualdad con un carácter

lo que queremos es aportar soluciones y lo que queremos es aportar mecanismos de funcionamiento de la política para que esto se haga reversible había algunas intervenciones me han recordado aquella frase

que estuve tan interesado tan ocupado en hacer la crítica que se me olvidó leer el libro

y falta de propuestas y nosotros queremos trabajar ahí por eso interpelábamos hace unos días por eso interpelábamos hace unos meses al lehendakari y por eso seguimos trabajando en esa dirección en estos momentos no solamente la recaudación en el país vasco está reduciéndose no solamente están en juego muchas inversiones

no solo está en juego la financiación municipal y la financiación foral sino que además está dentro de un bucle de tendencia económica bastante complicado ya se han tomado algunas decisiones a nivel internacional ya se han hecho advertencias a nivel internacional

ya se está advirtiendo que dos mil dieciséis va a acabar peor de lo que se había previsto que dos mil diecisiete apunta mal y ya los más aventurados empiezan a hablar de dos mil dieciocho

puesto de nuevo más dinero y durante más tiempo en circulación

en créditos sin interés ya se habla de rescatar deuda de empresas para que puedan seguir funcionando esto está en la política internacional y por lo tanto

que nos invitan a pensar que algo tendremos que hacer desde el autogobierno desde nuestras herramientas desde las posibilidades que tenemos en el país vasco para hacer política no podemos resolver el plano nacional e internacional

el plano que va más allá del continente europeo pero sí debemos de hacer con nuestras herramientas aquello que pueda contribuir a que los presupuestos se puedan llevar a efecto a que las previsiones

finalmente se puedan conseguir y en esa labor y en esa tarea estamos el autogobierno permite

un artículo que se titulaba alarma con la recaudación que

lo sugiero y ya advertía entre otras cosas que llevábamos tiempo con un informe

en el que se señala cuál es el fraude estimado en el país vasco bueno afortunadamente y no sé si por reacción pero

el gobierno se apresuró a anunciar que hoy colgaría el estudio que hoy lo trasladaría al parlamento que yo sepa no ha sido trasladado aunque ya hay unas declaraciones del diputado de hacienda de bizkaia en el que hace una estimación parece ser que

de este informe fiscal en el que ya dice que el fraude alcanza a una cantidad no voy a hablar sobre ella porque prefiero ver

que ha dicho la universidad al respecto y tiempo tendremos de hablar de esto pero efectivamente entre las posibles políticas que se pueden hacer

objetivos en la lucha contra el fraude fiscal la agencia tributaria de españa lo viene haciendo desde el año dos mil siete la agencia tributaria de navarra

mayoritario para que esto se hiciera así en euskadi

por parte de nuestro grupo en varias ocasiones todavía hoy no se fijan esos objetivos de lucha contra el fraude fiscal si son algunos los miles de millónes que se estiman de fraude fiscal sería razonable establecer fuente de ingreso en los presupuestos un objetivo de ingreso en los presupuestos como lo hacen otras agencias tributarias pues bien esa es una de las posibles

estímulos para el consumo se puede hacer también desde la política vasca una acción más decidida por la inversión pública por la creación de empleo público también por evitar que la elusión fiscal detraiga recursos

podemos tener mejor y mayor eficacia recaudatoria podemos facilitar inversiones privadas que a veces están dormidas porque nadie termina de tomar una decisión podemos recuperar negociación colectiva y recuperar salarios

es decir el autogobierno permite hacer políticas en el campo laboral permite hacer políticas en el campo económico permite hacer políticas en el campo de la lucha contra el fraude fiscal permite hacer políticas en la inversión en el empleo y en la inversión

y el problema es sí aquí se renuncia a hacer estas cosas o no los socialistas no renunciamos los socialistas nos comprometimos en su día

que se abrió paso a regañadientes de todo el mundo y que todavía hoy tiene detractores

era un objetivo de mejorar cual era la capacidad de hacer políticas públicas los socialistas nos venimos preocupando y ocupando y comprometiendo con que el país vasco tenga presupuestos porque a los ciudadanos hay que devolverles

mediante políticas públicas políticas sociales políticas que mejoren su calidad de vida en ese compromiso estamos los socialistas estamos en un compromiso constructivo no nos interesa la crítica por la crítica no nos interesa la diferenciación por la diferenciación no nos interesa tener la última frase bonita mágica o llamativa para caracterizar una situación si no que nos interesa que esto funcione

de que la fiscalidad cumpla sus objetivos y por eso en nuestras enmiendas de totalidad lo hemos señalado como seguimos en el compromiso de que los presupuestos cumplan los objetivos que se han establecido el consejo vasco de finanzas determinó una cantidad de ingresos nosotros pedimos en nuestra enmienda que hagamos una evaluación y una revisión de cómo está

en el presente año para que esa previsión que hizo el consejo vasco de finanzas se mantenga es decir nosotros no renunciamos a la previsión del consejo vasco de finanzas yo no sé si los demás quieren unos por crítica otros por inacción renunciar a esa referencia que hizo el consejo vasco de finanzas nosotros hoy no renunciamos

en una actitud de proponer respuestas y soluciones a este problema de revisar y responder nosotros no renunciamos a que el presupuesto

teniendo los recursos adecuados por eso también lo hemos situado en la enmienda y parece que esto tampoco gusta parece que es algo como excesivamente fuerte el que se diga que este parlamento se ratifica en las decisiones del consejo vasco de finanzas y se ratifica en las decisiones mayoritarias de este mismo parlamento

de nuestra enmienda y espero que esa esencia de nuestra enmienda no tenga ningún problema para ser revalidado en este debate

lo que viene a decir es mediante deuda o mediante déficit que se cumplan los objetivos que están fundamentalmente

del desarrollo económico de este gobierno es decir no pone en cuestión lo que se está planteando presupuestariamente lo que viene a plantear es que se cumplan aquellos objetivos que están señalados pues bien

una enmienda que perfectamente debe y puede ser asumida por el partido nacionalista vasco porque

estemos de acuerdo en mantener los objetivos del consejo vasco de finanzas y los objetivos presupuestarios bildu

con independencia de que también upyd ha planteado que estaba esencialmente de acuerdo con algunas de las enmiendas no sé si también se refería a la nuestra bien yo creo que hay posibilidades de

yo creo que hay posibilidades en este parlamento de que ratifiquemos el objetivo el compromiso de cumplir

y con los presupuestos acordados y para eso es necesaria una revisión
blanco y en botella eskerrik asko prieto jauna

zuhurtzia principio de prudencia horretara joko dugula

lehendakariak esaten duena invertir con rigor en lo importante eta nik esango nuke moduren batean kontzeptu lez prioridades eta invertir

este gobierno eta baita

hori da erantzuna que no vamos a recortar los pilares básicos baina gauza da zuk esan duzula que esa es una frase de cabecera eta gure ustez ez da una frase de cabecera

direla argi gelditzen da señor damborenea usted decía que parece ser que el pnv se equivoca últimamente siempre en el consejo vasco de finanzas y que ha cambiado de criterio en cuanto

sabe bien es la situación económica y el comportamiento de la economía y la incidencia que esto tiene en la recaudación dice

pueda decirnos eso porque la modificación del sistema tributario en españa ha causado un roto de cerca de cuatro mil millónes de euros ha sido que se ha equivocado o como usted dice equivocado entre comillas ha sido un cálculo mal realizado intencionadamente es curioso que usted

se equivoca cuando el incumplimiento del objetivo del déficit del dos mil quince de españa fue el previsto

y por tanto probablemente en julio cabe la posibilidad de que haya una sanción y

a julio para que no sea antes de las elecciones esos son los datos reales

de lo que ha pasado con el partido popular se equivocan o es que la situación económica ha cambiado y el comportamiento de la recaudación en algunos casos está modificándose señor maneiro no estamos hablando de estimaciones falsas no son estimaciones falsas

lo que hace en octubre son previsiones para el ejercicio posterior en base a datos del ejercicio anterior son previsiones

no ser honesto en la valoración de lo que se está haciendo son previsiones en base por ejemplo a conceptos como la recaudación de agosto del año anterior

o de la previsión de la evolución del producto interior bruto y señor

el problema es la recaudación decía usted por eso se planteó al inicio de la legislatura y acordamos una reforma fiscal que fue apoyada también por el partido popular que

es necesario evaluar y adoptar medidas en un futuro eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea

eskerrik asko mahaiburu andrea berriz ere la verdad es que cuando planteé esta moción

después de los últimos datos esperaba más de algunos grupos

la comunidad autónoma y el pse en su estilo de compromiso quiere aportar soluciones

que desde este grupo ha habido propuestas usted lo sabe hemos puesto propuestas encima de la mesa y hemos puesto propuestas también al partido socialista pero a mí lo que más me sorprende es la intervención del señor prieto de hoy que ha sido redonda

hoy me viene a decir en su enmienda y en toda su intervención a la revisión que quieren que se haga la revisión de la evolución de la recaudación con el fin de tomar medidas que permitan alcanzar las previsiones realizadas por el consejo vasco de finanzas y hace escasos cuatro días

está cayendo la recaudación y lo que está pasando es que hay que revisar toda la política fiscal porque está fallando la política fiscal y así lo recogieron todos los medios tengo aquí

pide revisar toda la política fiscal el pse sugiere al pnv una nueva política de impuestos ante la gran caída de la recaudación qué ha pasado del viernes a aquí señor prieto porque hoy ha venido usted aquí txintxo txintxo a decirnos que

no renuncian a que el presupuesto se cumpla en su totalidad qué ha pasado ya no hace falta modificar la política fiscal ya no es este gobierno como usted dijo usted dice que están blindadas y garantizadas las políticas sociales no es cierto

yo les veo a ustedes por el gobierno dubitativos les veo queriendo ganar tiempo les veo queriendo tapar la realidad de la recaudación con motivaciones y razones que no tienen ninguna validez política

señor prieto usted dijo eso el viernes aquí y ahora me viene con revisar la evolución tomar algunas medidas pero qué medidas si lo que usted me está diciendo al final es

que todavía tiene detractores sí nosotros desde el minuto cero se lo dijimos

y no da no da y usted lo sabe lo sabe perfectamente porque el viernes usted pidió

una nueva política fiscal pero hoy ya eso parece que no queda ahí que no renuncia a que el presupuesto se cumpla claro que no renuncia

usted firmó el presupuesto con el partido nacionalista vasco usted sabrá qué tipo de deudas o qué tipo de arreglos o qué tipo

espero y entiendo que serán básicamente las enmiendas que metió el partido socialista

ni rotondas y sus clubs de petanca también tengan financiación suficiente

muy corto su enmienda se queda muy corta y en mi moción en nuestra moción respaldemos el presupuesto del gobierno vasco en relación a la política del desarrollo sino que décimos que no aplique recortes adicionales

vienen con recortes desde hace cuatro años vienen con recortes

horretara beti zaudete invertir con rigor no es lo importante nik ez du esan bestelakorik

continúen apostando por las políticas de gasto inversión si nosotros llevamos cuatro años diciendo que estas políticas de gasto de inversión son erróneas tienen el norte en el sitio incorrecto evidentemente no vamos a entrar por aquí imposible y que siguen y que estas políticas se están dando pero es que los datos no acaban de salir que por más que se empeñen ustedes en repetir
una y otra vez datos macroeconómicos maravillosos que no lo son tanto amaitzen joan

hamar segundo eta bukatzen dut en la sociedad no se está percibiendo que la gente en sus casas no lo ve que la gente sigue teniendo problemas para llegar a final de mes

y ustedes erre que erre insisto han sido cuatro años perdidos cuatro años sin liderazgo

actividad su política económica es baldía no sirve para nada eskerrik asko pinedo andrea

muchas gracias señora presidenta yo creo que el partido socialista

que teníamos que no era el de la recaudación fiscal sino la ejecución o no de las inversiones previstas que ustedes aprobaron en el presupuesto

no las que aprobamos nosotros las que ustedes aprobaron porque señor prieto el problema no es la recaudación

eso es la consecuencia la consecuencia de la crisis económica la consecuencia del paro la consecuencia

por eso se recauda menos y si usted se fija en qué ha caído la recaudación en estos seis meses vera

y nos tendremos que preguntar por qué por qué la gente ha consumido menos nos lo tendremos que preguntar

por la inestabilidad política que se ha creado en españa durante seis meses y la gente ha dicho

a lo mejor digo por comentar y si usted se fija donde ha caído la recaudación en el cincuenta por ciento verá que es en la renta de capital

entre la documentación por qué se ha caído el cincuenta por ciento en las rentas de capital después de esa subida tan espectacular y fantástica que ustedes hicieron

la mitad la mitad que el año pasado y ese es el problema no es que las administraciones tengan menos dinero

más dinero no que tenga menos que es su propuesta hay que subir más los impuestos

esa es su propuesta pues no es la contraria y esa es nuestra propuesta y el partido nacionalista vasco nos decía que el tema es de prioridades

ninguna no en los trenes no en los tranvías no en las obras en las escuelas

cuál es su prioridad de inversión si es usted capaz de decírmelo le voy a decir cuál es el problema

en el año dos mil quince según la ejecución que nos han mandado

millónes de euros saben cuánto se ha incrementado la deuda en más de mil quinientos millónes de euros sabe usted qué significa eso

estamos cumpliendo algún criterio con estas cuentas que está aprobando este gobierno y usted me dice y el año pasado el gobierno de españa

que estamos en el estado de las autonomías y que cada uno tiene su competencia el gobierno de españa sí cumplió el criterio de déficit la seguridad social no por unas décimas

aquí los que quienes incumplieron fueron algunas comunidades autónomas

que espero que la haya la tendrán que pagar los que han incurrido en sus responsabilidades de incumplir esos criterios

cuando el reino de españa sufre una multa por el incumplimiento de una diputación de un ayuntamiento de una comunidad autónoma

esos son los responsables de pagarlo no nos hagamos trampas en el solitario y adjudiquemos a quien no tiene la responsabilidad se niegan a asumirlo luego aquí todo el mundo reclama más y cuando las tienen cuando se tienen las competencias

la culpa es de otro no no nos equivoquemos y me dice usted

claro que nosotros apoyamos la reforma fiscal oiga nosotros nos sumamos a corregir cosas que habían hecho especialmente cuando subían a los que menos rentas

por ponerle un ejemplo por ponerle un ejemplo porque nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo con eso pero ustedes están siguiendo con esos señores en la misma porque ahora como ya

para ver si las administraciones tienen más dinero para gastárselo en sí mismo y la deuda para pagar gasto corriente

en el dos mil quince encima hemos tenido la suerte la buena suerte en ese año

y nos hemos ahorrado cincuenta millónes de euros en el pago de intereses y así y todo dónde han ido a más gasto corriente

eso no es favorecer el empleo las cuentas que ha presentado el gobierno vasco no es favorecer el empleo y nosotros lo que le estamos diciendo y señor prieto

el mismo gasto que estaba previsto en octubre del año pasado es imposible
eso es lo que usted plantea eskerrik asko damborenea jauna mistoa

el problema es que creo que el verbo revisar tiene dos acepciones una de las cuales sería algo así como examinar o seguir la evolución de que creo que es lo que se plantea en la enmienda socialista y otra sería la de corregir yo creo que lo que plantea el grupo socialista es la autorización de la primera acepción cuando dice lo de la

en todo caso me da la sensación de que la señora gorospe quiere que este debate pase cuanto antes por eso está utilizando un perfil bajo poco habitual en ella y ciertamente también nos extraña que el señor prieto

critique que algunos critiquemos al gobierno vasco al consejo vasco de finanzas o incluso al partido nacionalista vasco por qué

de las decisiones erróneas o de los cálculos erróneos del consejo vasco de finanzas y de la aprobación de esas estimaciones y de la aprobación de esos presupuestos

el grupo socialista y por eso como lo sabe dice que no lo que hay que proponer son medidas de cara al futuro intentar que podamos cumplir las previsiones del consejo vasco de finanzas cuando ya se sabe que eso es prácticamente imposible o sin el prácticamente

nos engañó o se equivocó lo lógico es pedirle responsabilidades políticas

nos mintió como si nos engañó o se equivocó simplemente porque no supo leer la evolución económica que nos venía tanto en una situación como en la otra lo que tiene que hacer el consejo vasco de finanzas el partido nacionalista vasco las diputaciones y el gobierno vasco es reconocer esos

contar la verdad ahora en relación a la situación económica hay que asumir los errores del pasado porque como decía antes muchos

que las estimaciones previstas en cuanto a la recaudación eran poco menos que fantasiosas y por otro lado que el gobierno de españa se equivoque

el partido socialista de euskadi el gobierno vasco pueda igualmente equivocarse o mentirnos no puede ser una cosa no justifica la otra

decir la verdad lo segundo acertar es decir los responsables políticos tienen que acertar si no aciertan tienen que asumir sus responsabilidades incluso aunque sean del partido nacionalista vasco si estimaron unos ingresos presupuestarios

algo tendrán que decir el partido nacionalista vasco algo tendrá que decir que la evaluación económica ha cambiado bueno ya pero es que eso también tuvieron que tenerlo en cuenta y ahora se nos dice que efectivamente

tiene que ver con el último trimestre del ejercicio del dos mil quince tiene que ver con la evolución del iva

venden más fuera y por lo tanto crecen sus exportaciones

los oyentes en fin pero esas cosas evidentemente un responsable político tiene que conocerlas antes y si no las conoce actuar con prudencia

falsear las estimaciones del futuro falsear los presupuestos y lo que no puede hacer tampoco es que la oposición se mantenga callada ante esos errores o ante esas mentiras evidentemente yo creo que esto es muy

de las diputaciones forales del partido nacionalista vasco y del partido socialista de euskadi que ustedes tienen que asumir y luego está qué hacemos para

que se tomen las decisiones correctas de aquí a final de año

no recortes en ningún ámbito que tenga que ver con el estado del bienestar la sanidad la educación el gasto social

lo que pasa es que posiblemente sea imposible teniendo en cuenta el presupuesto que tenemos va a ser imposible por lo tanto el gobierno vasco tendrá que explicarnos

nosotros tenemos algunas ideas en relación a dónde se pueden producir determinados ajustes o recortes en todo aquello que sobra en euskadi

en todas esas instituciones que sobran en el país vasco en todo lo que tiene que ver con e i te be

en todo lo que tiene que ver con la política lingüística que alcanza los más de cien millónes de euros ahí es donde ahora se podría recortar plantear ahora una reforma fiscal tampoco tiene ningún sentido porque esto tendría efectos de cara al próximo

ahora por lo tanto en primer lugar efectivamente pedir responsabilidades políticas a quienes nos han mentido y o han en sus cálculos de cara al futuro es decir en relación a las estimaciones de ingresos y segundo exigir medidas al gobierno

en todo eso que consideramos importante estado del bienestar inversiones productivas todo esto que sirve para

empleo estable digno y de calidad por esas razones votaré la enmienda que he presentado yo mismo

yo le agradezco mucho el interés que se toma por seguir

y además el eco tan formidable que me hace cuando las reproduce aquí con lo cual

me lo tomo pero quiero recordarle que estamos en esta cámara debatiendo esto por una iniciativa suya entonces usted es la primera que marca los términos del debate y a partir de ahí los grupos nos vamos posicionando

que el parlamento vasco insta al gobierno a que no aplique ningún recorte adicional en el presupuesto del dos mil dieciséis especialmente en los apartados de desarrollo y de recuperación económica utilizando para ello la opción

es decir usted dice que el parlamento vasco no aplique ningún recorte

no aplique ningún recorte luego acepta el presupuesto del año dos mil dieciséis porque no hace ninguna variación más sobre el presupuesto de dos mil dieciséis además dice que tiene que ser

y además dice que tiene que ser mediante una política de endeudamiento bien nosotros lo que décimos frente a eso es que efectivamente no estamos de acuerdo

los objetivos que están previstos en el presupuesto por eso planteamos que hagamos una revisión de cómo está la evolución en este momento y por eso plantemos una ratificación en los objetivos que se planteó de recaudación el consejo vasco de finanzas

y yo hoy quiero ver aquí yo hoy quiero ver aquí si el partido nacionalista vasco renuncia a los compromisos del consejo vasco de finanzas y renuncia a los objetivos que se han aprobado en los presupuestos

estará renunciando a los objetivos del consejo vasco de finanzas

a los objetivos del presupuesto y entonces saldremos de una duda metafísica

del gobierno y de otros cargos públicos del partido nacionalista vasco como el diputado

donde se nos está diciendo por varias veces que lo que tenemos que hacer es esperar que hay que tener prudencia que hay que esperar que hay que tener prudencia y que hay que esperar y entonces bueno vamos a ver si esa espera y esa prudencia

o si esa espera y esa prudencia que se plantea esconde alguna cosa que

hoy la vamos a debatir partido socialista lo que dice es

da márgenes para tomar decisiones políticas económicas que recomponga esa recaudación y hemos planteado siete propuestas aquí en esta cámara por eso hemos venido con una actitud propositiva

de mera crítica hemos venido con una actitud propositiva de decir el autogobierno permite hacer más política económica más política de inversión más política de empleo más política de recuperación de negociación colectiva más política de recaudación eficaz

eso permite el autogobierno no necesitamos esperar para tomar esas medidas para reforzar esas medidas y una cosa es la revisión de la reforma fiscal

esta legislatura en el marco del término de esta legislatura y otra cosa es la revisión de la recaudación del año dos mil dieciséis

nos indicará cuál ha sido su aplicación cuál ha sido su eficacia lo que sea pero la recaudación que es lo que está cayendo que es lo que está fallando

y estamos en el inicio del mes seis quedan otros seis meses y por cierto razonablemente el semestre que queda debiera ser de una evolución económica mejor y en este país en euskadi está ocurriendo que los indicadores macroeconómicos según el gobierno van bien como el crecimiento del producto interior bruto y el crecimiento del empleo la recaudación va mal y esto no cuadra y por lo tanto nosotros décimos hay que hacer una revisión ya de los objetivos del consejo vasco de finanzas de qué está pasando en la recaudación y de con el autogobierno qué medidas políticas se pueden tomar para sacar

hoy quiero ver y no quiero lamentar quiero ver si el partido nacionalista vasco va a votar ya definitivamente en contra de los objetivos del consejo vasco de finanzas y en contra de los objetivos que en este parlamento por mayoría y con nuestro concurso

no va a votar en contra de los objetivos del consejo vasco de finanzas nosotros no renunciamos en absoluto a lo acordado en el consejo vasco de finanzas pero usted sabe perfectamente que lo que usted ha escrito

no se ajusta a la realidad digamos usted sabe perfectamente que lo que se hace en el consejo vasco de finanzas son previsiones

usted conoce pero además he explicado en mi primera intervención y que cualquier modificación que se pudiera hacer fiscal en este momento en ningún caso

de forma que tuviera efectos en el dos mil dieciséis muchas de las razones por las que ha caído la recaudación son imputables a normativa de territorio común a la normativa que se aprueba en el caso de iva y también en algunos aspectos de sociedades pero tampoco en renta ningún impuesto

y reformas en este momento ni aunque se hicieran con carácter de urgencia de forma que sus efectos se produjeran en el dos mil dieciséis y eso usted lo sabe

eta en cuanto a las por cierto en cuanto a que el producto interior bruto crece y sin embargo la recaudación no tiene el mismo comportamiento a la que se ha referido usted prieto antes el señor maneiro ha hecho un repaso de lo que esta mañana el diputado de hacienda de bizkaia los argumentos que ha aportado en la entrevista que se le ha hecho en radio euskadi

oportunidad de escucharle las exportaciones no están sujetas a iva no aplican el iva y sin embargo

esa es una de las razones por las que ha habido modificaciones en las previsiones de la recaudación del impuesto sobre el valor añadido

gure herritarrentzat y para terminar señor damborenea

usted hablaba de prioridades de subir y bajar impuestos tiempo al tiempo ustedes con la bajada de impuestos

ahora que están en campaña electoral o que esta noche empiezan la precampaña

ahí está ustedes dicen que van a bajar los impuestos tiempo al tiempo ustedes no van a bajar los impuestos y
maneiro isiltasuna mesedez no es una cuestión no es una cuestión como usted ha dicho de que

haya optado por el perfil bajo para que este debate pase sin pena ni gloria en absoluto creo que es tan importante de lo que estamos hablando creo que es tan importante que hablemos y defendamos el esfuerzo colectivo

que la sociedad vasca está haciendo para eliminar y para luchar contra los factores de desigualdad más importantes que hay en este sistema que estoy absolutamente convencida de que la gente nos pide colaboración cooperación y abandonar la confrontación

un buen sistema de salud un potente sistema educativo y la lucha fuerte contra la exclusión social eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea

gracias presidenta bueno días

consejeros bueno esta es una

en relación con una conferencia que el secretario general de

pronunció el pasado veintiséis de abril en el parlamento europeo y en ese sentido mi grupo pues con este tipo de iniciativas lo que quería es mostrar una protesta

por las referencias tan injustas como provocadoras y falaces que realizó en relación con los terroristas miembros de eta que están en la cárcel o que están

algunos podrían pensar que es darle publicidad o propaganda

pero estas cuestiones nosotros entendemos que en una cámara como esta no pueden pasar desapercibidas

y en ese sentido por eso viene la iniciativa porque calificar

sigue siendo además del permanente constante estribillo machacón de la izquierda abertzale pues es mentira y una calificación que insulta a los presos políticos que hay de verdad en el mundo los presos políticos que hay en venezuela como ayer

en las cárceles de marruecos o las del sahara occidental ocupado

pero en españa lo que hay son presos por delitos como el asesinato la extorsión el secuestro la pertenencia a banda terrorista el crimen organizado mafioso no hay

al margen de las falaces justificaciones en personas que decidieron sumergirse en el crimen y la búsqueda del exterminio del no nacionalista

un etarra es tan político

shaolín o el violador del ensanche

fue la verdad es que eso sí al margen de sus calificaciones en relación con

novedosa pero sí que quiso remarcar esa provocación la búsqueda del blanqueamiento de la historia criminal de la banda a la que

las obsesiones habituales la hostilidad contra españa la hostilidad contra francia

la dispersión de los presos de eta el

conflicto o el culto

conferencia el culto a su personalidad ese factor soberbia que apareció de una manera desbordarte eso sí eta indemne del discurso eta como actor de la situación incluso o sea algo verdaderamente indecente y todo ello señorías sigue siendo una gran provocación para las víctimas como se encargaron de recordarle en sede parlamentaria las hermanas de tres asesinados por eta y en concreto maite pagazaurtundua y teresa jiménez becerril y de nuevo

en portavoz de eta y del victimismo de la situación de sus miembros ya hemos hablado de los presos pero también

en sus consideraciones a los etarras huidos de la justicia como refugiados otro sarcasmo y otra provocación

para los refugiados de verdad en el mundo por causas de las guerras por causas de las dictaduras un insulto

y para aquellos que huyen del exterminio causado por el terrorismo islámico por el estado islámico o para los refugiados de campos como el de dadaab

y somalia un insulto también vuelvo a repetir para esos saharauis en los campos de refugiados

porque igual se refiere como refugiados quizá igual se refiere como refugiados a los huidos de eta que viven bajo el amparo

de maduro igual esos son los refugiados que no han respondido aquí por sus crímenes

uso de su libertad de expresión para decir lo mismo que siempre ha dicho su defensa de eta

hacia españa hacia francia nada nuevo salvo la permanente

a las víctimas hemos presentado una iniciativa una proposición no de ley muy clara también entendemos que otegi trató en su intervención de blanquear esa trayectoria criminal de eta bueno eso lo hace a menudo

y con una expresión eufemística e insultante para las víctimas del terrorismo

este tipo de manifestaciones se consideran mayoritariamente como ofensivas para las víctimas del terrorismo y como no ciertas en relación con lo que representa hoy la organización terrorista eta y por eso nosotros planteamos una

claro en relación con las injustas declaraciones efectuadas por el secretario general de sortu en bruselas y décimos que el parlamento vasco

no son refugiados y que los presos de eta no son presos políticos

y haber dicho más cosas pero nosotros entendimos que una declaración de estas características un mensaje claro concluyente en relación con que los miembros de la organización terrorista

es muy fácil de aprobar por los grupos parlamentarios de esta cámara por

todos los grupos parlamentarios de esta cámara salvo lógicamente el que respalda las actuaciones

respaldaremos y apoyaremos cuando se vote y con las enmiendas de totalidad

como la del señor elola que también dice cuestiones similares a las que nosotros defendemos esta es la iniciativa pues que quiere ser una protesta ante tanta injusticia y ante

atentos a las excusas que pueda poner el partido nacionalista vasco para no decir lo que el partido popular plantea en esta sencilla pero clara y contundente moción vamos a ver lo qué dice el partido nacionalista vasco

decir que los miembros de la organización terrorista eta no son presos políticos y que los huidos de la justicia española no son refugiados hay veces que se ponen unas excusas y otras veces se ponen otras escucharemos atentamente cuáles son

concreta que va al grano y no deja lugar a dudas nosotros hemos querido presentar una enmienda que trata de

popular el grupo socialista ha hecho lo mismo pero en lo fundamental estamos de acuerdo lo triste es que este no vaya a decir hoy que los presos de eta no son presos políticos y lo triste es que este parlamento no vaya a decir hoy que los huidos de la justicia española miembros de eta no son refugiados esto es lo triste es volver a comprobar que esto se va a producir como consecuencia de que el partido nacionalista vasco votará en contra de estas iniciativas el lehendakari ni siquiera está

nosotros sí estamos de acuerdo con la moción planteada por el grupo popular estamos también de acuerdo con la enmienda planteada por el grupo socialista votaremos todas ellas y votaremos también la enmienda de upyd hace algunas semanas yo le explicaba al lehendakari

se desplazó al parlamento europeo y participó en diversos actos de propaganda política al objeto de blanquear su propia historia de relación continuada con eta y la historia del conjunto de la izquierda abertzale y de la propia banda terrorista básicamente para esto fue

contar mentiras a la opinión pública europea durante su gira propagandística decía yo realizó varias afirmaciones que entendemos suponen un insulto

del terrorismo y al conjunto de la sociedad democrática que el parlamento vasco y el propio lehendakari como representantes de los ciudadanos vascos no deberíamos dejar pasar

y no haremos distinciones entre unos y otros porque el sufrimiento se mide con la misma escala para todos lanzó

llegando a señalar algo que nosotros pensamos que es inaceptable que todos los presos políticos deben salir decía él a la calle y los deportados y refugiados deben regresar a casa cuando un conflicto ha terminado no se mantiene en prisión a quien ha participado en él todo esto era lo que decía

nos parece que son además de mentira un insulto directo a las víctimas del terrorismo y a la sociedad democrática por eso este gobierno el partido nacionalista vasco también y el lehendakari especialmente debería decir que no está de acuerdo con esas afirmaciones básicamente lo que dijo en aquella interpelación fue que en fin

pueda hacer uso de su libertad de expresión nosotros esto consideramos que es algo

inaceptable este parlamento tiene algo que decir y el lehendakari también y debe decir que los presos de eta no son presos políticos y que los huidos de la justicia no son refugiados esto es lo que nosotros planteábamos en aquella interpelación y planteamos hoy con esta moción

en la eurocámara un grupo de demócratas de personas dignas se concentraba junto al salón de plenos para denunciar la presencia de otegi y guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terrorismo un acto organizado por dos eurodiputadas maite

y teresa jiménez becerril quienes dieron otra vez un ejemplo de dignidad

a las mentiras del expreso este parlamento por lo tanto

deberíamos decir básicamente lo que dice la moción del grupo popular o lo que dice la enmienda socialista o lo que dice la enmienda de upyd que no estamos de acuerdo que cuando alguien miente e insulta a la sociedad vasca de esa forma este parlamento tiene que responder de manera contundente

para defender sus instituciones para defender la verdad de los hechos ocurridos para defender a las víctimas y en definitiva para defender a la sociedad a la que representamos

partido nacionalista vasco no se va a sumar por intereses de todo tipo fundamental es que no se va a sumar nosotros lo que planteamos es que este parlamento declare que los presos de la banda terrorista eta no son presos políticos

no son refugiados que este parlamento rechace

su visita al parlamento europeo y queremos que este parlamento se comprometa a denunciar cualquier intento de blanqueamiento de la historia criminal de eta y a proteger la dignidad de las víctimas del terrorismo y de la sociedad vasca algo perfectamente razonable algo perfectamente de sentido común no hay que decir mucho más que dos o tres frases para que la posición de este parlamento pudiera quedar clara sin embargo el partido nacionalista vasco

de todas estas iniciativas unos por unas razones otras por otras razones quizás semejantes lo cierto es que este parlamento no va a ser capaz de decir que

de la vulneración de una serie de derechos humanos presos como consecuencia haber cometido una serie de delitos tipificados en el código penal nosotros en todo caso mantenemos esta posición por lo tanto
apoyaremos la moción del grupo popular la enmienda de upyd y también la enmienda socialista gracias eskerrik asko maneiro jauna

efectivamente los socialistas tenemos serias dudas de que aporte algo positivo a la tarea que tenemos pendiente de superar los daños que la violencia terrorista ha causado en nuestra sociedad el que nos dediquemos aquí a censurar o defender la gira promocional que ha hecho el señor arnaldo otegi en las distintas cámaras

ez behartu nada ni nadie obligó a matar y amenazar a quienes pensaban diferente y en esa situación están estamos cientos y miles de personas ahora bien tengo mis dudas como les decía

sean útiles para asentar la etapa post eta sobre bases firmes sobre una memoria cierta de lo que realmente ha ocurrido una memoria

este es un trabajo que tenemos que abordar sobre todo en el seno de nuestra sociedad en la calle en el debate público en los medios de comunicación en la escuela en los libros

porque la memoria histórica tiene que ser ante todo eso historia e histórica debe atenerse a los hechos y a su contexto no puede supeditarse

a la interpretación siempre interesada y parcial que quieran darle quienes estuvieron implicados personal y políticamente

por supuesto que esta cámara debemos reiterar que aunque todas las víctimas sean iguales no pueden ponerse en el mismo plano a los que mataron y a los que fueron asesinados que después de la amnistía de mil novecientos setenta y siete no ha habido presos políticos

política o no y que las únicas personas que merecerían en nuestro país el nombre de refugiados serian aquellas que tuvieron que marchar

de eta pero estos conceptos que los socialistas tenemos muy claros no se acreditan ni se imponen mediante mayorías parlamentarias y sería lamentable que otra vez nos limitemos a reiterar aquí posiciones que nos sabemos de memoria

para dejar definitivamente atrás la página negra del terrorismo unos mucho más que otros todo hay que decirlo

este tema a debate a esta cámara no tenemos ningún interés en regalarle

que haya podido conseguir en bruselas o en cataluña pero dado que el debate ha entrado en este pleno queremos que al menos le saquemos algún provecho

queremos ir más allá de la denuncia de la gira de promoción y de las declaraciones hechas en ellas por el secretario general de sortu

lo que puede y debe unirnos por eso hemos planteado nuestra enmienda rechazar cualquier intento de ocultar el sufrimiento vivido en este país

de la injusticia de la violencia y del daño causado así como el reconocimiento

del derecho a la verdad la justicia y la reparación y por supuesto admitir claramente que nada justificada la violencia y que es una

presentar cono víctimas ideológicas a los terroristas condenados por la justicia o a los que huyeron para no ser detenidos horrexegatik

berbera errepikatu behar por lo tanto lo que ya está dicho y aprobado por este parlamento no es necesario repetirlo ya está dicho y aprobado en aquel debate quedaron claras las opiniones de todos los grupos sobre qué son presos políticos

aplicable o no esa definición pero para que no quede ninguna duda al respecto de la posición de mi grupo y ante la insistencia

el partido nacionalista vasco coincide con naciones unidas en su definición respecto a los presos de eta no considerándolos presos de conciencia o presos políticos sino presos de motivación política que impulsados por objetivos políticos se han dedicado a quebrantar la ley

a poner bombas a disparar y a utilizar la violencia o en su caso han dado amparo y cobertura a dichas actuaciones los presos de eta han sido juzgados y condenados por la comisión de delitos relacionados con la actividad terrorista de eta eta siempre ha querido condicionar y alterar la situación política sus acciones armadas los atentados y asesinatos y perseguido un efecto político de ahí que sean personas que con objetivos políticos delinquen decíamos entonces queda claro por tanto que para el partido nacionalista vasco los presos de eta no son presos políticos podemos repetirlo o se puede repetir tantas veces como ustedes quieran

ni nuestra posición ante ella no vamos a blanquear la historia de eta no queremos

y ya hemos comprobado que no funciona que no sirve para construir la convivencia pero no vamos a repetir machaconamente los mismos eslóganes cada vez que a alguno de ustedes les parezca necesario o interesante ni cada vez que otros pretendan insistir en un relato falso

las bases sobre las que se va a asentar la convivencia en euskadi ya fueron fijadas por la ponencia de paz y convivencia la legislatura anterior y han sido ratificadas en esta legislatura por este pleno

no le da más valor en todo caso lo banaliza si los principios son claros y si están bien asentados no es necesario reiterarlos machaconamente

conforme a los tiempos y a los intereses partidarios de unos u otros por eso nuestra enmienda pretende huir de eslóganes que afiancen a cada uno en su trinchera busca avanzar hacia el encuentro entre diferentes hacia la convivencia basada en la memoria sí

llama a la colaboración constructiva a todos los actores políticos sociales e institucionales para caminar hacia la normalización social y política en euskadi llama a desarmar el lenguaje a retirar de nuestro lenguaje político

o aquellas que pretendan otorgar justificación política a las violaciones de derechos humanos y llama también a normalizar la política penal y penitenciaria

por un lado y asumiendo por otro las vías legales e individuales para acceder a los beneficios penitenciarios llama en definitiva a mirar hacia delante

no olvidando o blanqueando lo sucedido pero sí buscando un futuro mejor

que evite repetir las experiencias traumáticas de nuestro pasado reciente ez dugu lubakietan jarraitu nahi ezberdinen arteko elkarteratzera

gracias presidenta señor

le incomoda el debate o que el debate se reproduzca pero yo creo que lo incómodo

que generan otros que lanzan otros y que nosotros no nos movamos y que nosotros no nos reafirmemos en nuestras posturas y que nosotros no exijamos la verdad usted ha hablado de la falsedad de algunos discursos efectivamente pues eso es lo que queremos remarcar nosotros usted va a tener

de mi iniciativa porque la iniciativa si además usted ya votó lo mismo que antes usted va a votar en contra

terrorista eta no son refugiados y que los presos de eta no son presos políticos bueno si eso ya lo

es que sereafirme en esa cuestión es

es tan clara esa iniciativa que lo que pretende es

las cosas claras y desde luego no humillar a las víctimas que es lo que ellas han reclamado en relación con ese discurso en relación con esos planteamientos

calificativos a los presos o los huidos de eta

en este parlamento sobre eta y hemos hecho y desde luego no era para

pues todavía tenemos que seguir hablando de alguna cuestión de sus efectos y no como los que

causan daño que causan dolor que son injustos que no son verdad que no son veraces pues esa es la cuestión que a nosotros nos trae

como esa y alguien ha hablado de la etapa pues eta ha sido el señor elola en la que estamos bueno efectivamente se podría decir así no

nos vamos a resistir nosotros y mi grupo se va a resistir a ello

hay muchas más cuestiones pendientes pero nos hemos querido concretar en una cuestión que la sociedad y que las víctimas han percibido como negativa como injusta como falsa y traerla a este parlamento y desde luego

para que todos los grupos quitando los que apoyan ese tipo de discurso ese discurso en concreto y lo que lo realizan pues la apoyen por eso mismo hemos hecho ese esfuerzo

que por ahí tenemos que caminar usted

en ese sentido pero mezclándolo también con necesario para la normalización de la convivencia

gráfica como cuestión expresa declaración parlamentaria la convivencia claro que la tenemos que trabajar entre todos

somos partidos políticos que tenemos nuestros programas y que queremos vivir en paz y siempre lo hemos querido la convivencia nosotros la hemos impulsado siempre

es que haya pronunciamientos claros en relación con cuestiones claras y legítimas y que además nos exigen las víctimas bildu

de portavoz pero no cambia de fondo no cambia de discurso para bildu esta legislatura acaba como empezó con bildu reafirmándose en la justificación de eta

sin condenar los crímenes de la banda señor urizar

lo aguanta todo pero usted dice que tiene respeto a las víctimas de eta

pero señor urizar todas las víctimas todas

no condena hoy antes sí y hoy no lo que provocó su dolor o sea que yo no sé exactamente

las víctimas de eta no sé exactamente qué respeta yo creo que es un discurso falso que usted realiza en relación con las víctimas

usted sigue valorando y sigue apoyando lo que causó su dolor y por supuesto que todo este proceso del que usted habla

que no haya ganadores y perdedores claro que tiene que haber ganadores y perdedores en todo este proceso por supuesto que tiene que haber ganadores y perdedores los perdedores tienen que ser los terroristas

los huidos los presos y los que puedan estar por aquí

los perdedores y los ganadores pues tiene que ser la sociedad democrática tiene que ser euskadi

en el mismo discurso que al principio señor urizar muchas gracias eskerrik asko barrio jauna maneiro jauna

los representantes de eh bildu respaldan a este personaje y las palabras pronunciada por este personaje esta es la realidad de los hechos

justifica el asesinato selectivo de ochocientos cincuenta y seis seres humanos ingresó en eta político militar en mil novecientos setenta y siete y en eta militar en mila bederatziehun eta laurogeita bat

proponían un proyecto que no respeta las reglas de la democracia fue condenado a seis años de prisión por secuestrar al director de la fábrica michelin luís abaitua cero es el número de veces que ha condenado los asesinatos de eta

fue injusto cumplió quince meses de prisión por dar las gracias a todos los gudaris que han muerto cometiendo atentados en dos mil once la audiencia nacional le condenó a diez años de cárcel

terrorista cero es el número de veces que ha reconocido que la violencia de eta fue innecesaria a este personaje defienden ustedes hoy a este personaje defienden ustedes hoy a este personaje su trayectoria y las palabras recientemente dichas en el parlamento europeo

las palabras dichas por este personaje o por no censurarlas contundentemente por parte de este parlamento que representa a la sociedad democrática vasca a mí al menos se me caería la cara de vergüenza

y nosotros no podemos estar en silencio cuando este personaje se pasea

diciendo que los presos de eta son presos políticos es algo inaceptable no importa que esta parlamento dijera hace dos tres o veinte años que

hay que repetirlo tantas veces como sea necesario especialmente ahora que las palabras de

verbalizadas hace apenas unas semanas en el parlamento europeo y este parlamento que representa a la sociedad vasca no puede permanecer callado no podemos ser

y las víctimas del terrorismo no podemos ser equidistantes entre este personaje y la sociedad democrática no podemos permanecer callados ante esta afirmación decía el señor urizar que respetamos a las víctimas no

si ustedes consideran que los presos de eta son presos políticos están insultando y despreciando

porque lo que vendrían a decir es que sus asesinatos estuvieron bien y están justificados ustedes tienen que decir cualquier demócrata debería de decir que los presos de eta están en la cárcel por haber cometido delitos perfectamente tipificados en el código penal y que por eso mismo no son presos políticos

y los hay muchos en todo el mundo pero no en euskadi ni en españa por estar en la cárcel haber dado su opinión política en relación a determinados asuntos no es el caso de los presos de eta los presos de eta están o estuvieron en la cárcel por haber cometido delitos perfectamente tipificados en el código penal no basta con decir señor iturrate que está ya dicho declaraciones son recientes y este parlamento que debate de asuntos que tienen muy poca importancia todos los días del año debe poder posicionarse de manera rápida y contundente en relación a esta cuestión usted podía haber bajado a la tribuna si esta asunto realmente no le importa

que se repite en el tiempo simplemente haber dicho que está de acuerdo con lo que plantea el señor barrio

y votar a favor de ella simplemente esto qué importa que se haya dicho ya hace dos o tres años cuando estas declaraciones acaban de ser otra vez pronunciadas por

no son eslóganes esto que se plantea no es un eslogan

un eslogan sino una declaración de principios y nuestro compromiso con la verdad y para enfrentar las mentiras que

vender en europa o en el mundo siempre lo han hecho han tratado de vender sus mentiras en medio mundo y lo que los demócratas vascos tenemos que decir

y que mienten mienten con la intención de blanquear su propia historia de acompañamiento a eta y la propia historia criminal de la banda

escribía no hace demasiado que los terroristas de hoy puede que mañana

depende de quién escriba la historia por eso es tan importante que seamos los demócratas quienes escribamos la historia parece ser que el partido nacionalista vasco y el lehendakari que ni siquiera están presentes dan por buenas esas inadmisibles declaraciones

considera que este asunto no es prioritario que no es importante que ya está todo dicho

apoyamos la moción defendemos nuestra moción y nos reiteramos en nuestros postulados democráticos de defensa de las víctimas y de la sociedad vasca y española democrática

la violencia siempre es el peor camino en cualquier situación eta esan zuen baita ere

presidente andrea señor maneiro decía usted en

repetida era una reposición en ese papel

refiriéndose a nosotros que se le caería la cara de vergüenza si se comportase o si fuese a tomar la decisión que vamos a tomar nosotros qué se le va a caer la cara de vergüenza a usted señor maneiro a usted no se le cae la cara de vergüenza nunca usted ha venido aquí ha calumniado

a cargos públicos del partido nacionalista vasco que ha quedado absolutamente demostrado

y a usted no se le cae la cara de vergüenza nunca jamás por lo tanto no diga que se le caería la cara de vergüenza porque tiene usted para eso y para mucho más

era tan previsible lo que iban a decir que es que he respondido a cada una de sus acusaciones antes incluso de que las hiciesen pero le voy a decir

déjese de eslóganes déjese de propaganda barata déjese de mandangas en definitiva y póngase al tajo traiga usted algo

plantee medidas concretas sea proactivo póngase a trabajar mire le voy a dar una idea usted tiene paralizada desde hace unos meses una proposición no de ley

a aprobar una ley una directiva europea para tratar a las víctimas del terrorismo

y la ha retirado ya dos veces del orden del día traiga cosas que son

eslóganes y sobre todo de utilizar las palabras no como palabras sino como cuchillos para lanzárselos al oponente político que es lo que hace usted normalmente decía el señor barrio me decía a mí que voy a tener un problema si voto en contra

que vaya a tener ningún problema por ello porque no lo he tenido hasta ahora en todo caso si usted lo que quería realmente era una declaración conjunta por qué no lo ha propuesto yo era enmendante podía haber llamado

o usted qué quería una trágala no no si su declaración ya la conozco si un eslogan de dos frases un eslogan publicitario ya lo conozco si ya lo hemos aprobado en este parlamento pues ya está dicho y no lo voy a repetir cada vez que a usted le convenga

póngase a trabajar llame por teléfono intente acordar intente consensuar porque usted no le he llamado yo para ver si había alguna transacción al respecto

como al señor maneiro que aquí hubiese un acuerdo aquí lo que le interesaba a usted es

los términos y el lenguaje como si fuese una piedra al oponente político eso es lo que usted buscaba y eso es lo que con nuestra ayuda no va a conseguir yo no sé si voy a tener un problema o no parece a la vista de lo que piensa esta sociedad sobre nosotros

en los últimos años y a la luz de las encuestas parece que no va a ser un problema tan grave como el suyo señor maneiro en todo caso

que me cuesta distinguir en todo caso no me preocupa si lo tengo el problema porque en este tema no buscamos la comodidad no buscamos los parabienes de nadie tampoco los suyos no buscamos un espacio cómodo buscamos avanzar buscamos construir

buscamos construir una sociedad que progrese una sociedad que proteja y reconozca a las víctimas y que sea capaz de construir su futuro mirando bien al pasado

con sus eslóganes y con su repetición machacona

artean egiten da eta hitzez hitz hala dio araudiak el candidato será elegido preferentemente entre profesionales de radio televisión española

de veintisiete de marzo de modificación de la ley de creación del ente público radio televisión vasca

que modifica el artículo décimo de la ley original y en su punto tercero dice que el presidente del consejo de administración será el defensor del espectador y deberá recibir tramitar y responder cuantas quejas sugerencias y propuestas le puedan dirigir en relación a las funciones atribuidas al ente público y sus sociedades en los términos que se establezcan reglamentariamente lo cierto es que durante estos años

desarrollo reglamentario no se ha producido pero también es verdad que esta legislatura

intensamente sobre todo a partir de enero de dos mil quince en esta comisión han participado representantes de los consejeros elegidos a propuesta de los grupos políticos presentes

y de un representante de las entidades y asociaciones representadas en el mismo la labor de esta comisión ha sido encomiable y respetando la función del consejo en este asunto solo diré que espero que el consejo de administración de e i te be apruebe en breve el proyecto de reglamento en el que se desarrolla ampliamente la función de la defensoría de las personas usuarias de televisión

no nos oponemos a revisar y mejorar la figura de la defensoría del usuario pero en la ley se dice

por lo que estos cambios implicarían modificar la ley y creo que todos somos conscientes de que en este momento sería bastante

de momento pensamos que lo urgente es dar a conocer a todos los vascos y vascas que disponen de un canal para plantear sus quejas sugerencias y propuestas que pensamos serán muchas dado los niveles de desafección a los que se está llegando sobre todo en etb porque estamos convencidos que a la ciudadanía le interesa que el dinero con el que se sufraga este servicio público de radio televisión se traduzca en una programación que merezca su atención o que le ofrezca prestigio

le interesaría que con esos presupuestos se colaborará con la industria audiovisual vasca en la generación de productos de calidad algo que no ha hecho esta dirección ni siquiera lo ha intentado pues el grueso de ese capítulo se gasta en productoras que funcionan más como subcontratistas de mano obra para realizar programas

sinceramente pienso que de conocerse como debiera la figura del defensor del usuario este recibiría multitud de quejas por cómo se abordan los informativos porque estoy convencido de que muchos

ni siquiera diré que a la ciudadanía nacionalista que más allá de sus sentimiento y su entidad también están interesados como los no nacionalistas

y en las propuestas que haya para cambiar las cosas y todas estas cosas que interesan a la ciudadanía suponen otro modelo de radio televisión pública es lo que algunos especialmente los socialistas

con el afán de intentar corregir el rumbo no es la crítica política lo que ha deteriorado etb lo que ha deteriorado etb es que los vascos y vascas han dejado de ver su tele el deterioro viene porque la dirección sembró de minas el campo de la confianza con los representantes de los trabajadores

admitamos incluso los que hubieron que esperar hasta el pasado lunes para hacerlo que hay que cambiar de modelo lamentamos el tiempo perdido porque solo ha contribuido a hacer más grande el agujero pero si conseguimos comprometer la voluntad de todos los partidos en abordar esta reforma podremos acabar

de la figura del defensor del usuario de etb es un elemento más

que trabaje como un verdadero servicio público una e i te be objetiva competitiva eficiente

atender a la realidad sociolingüística que respete el principio de igualdad el pluralismo político religioso y cultural una e i te be que se aleje de las coyunturas políticas en la calidad y la oferta diferenciada que apueste por las capacidades de sus profesionales

con una estructura empresarial más ágil y una dirección profesional que no pierda el sentido de lo público y la necesidad de rendición de cuentas permanente a la sociedad

la que presentamos a la sociedad vasca y a todos los grupos políticos hace más de un año

su iniciativa no ha servido para crear la defensoría del usuario que ya está creada pero al menos es posible que a partir de hoy muchas más personas conozcan que existe y puedan elevar sus aportaciones y quejas a la misma

conozca su derecho a contribuir para mejorar un servicio público que lo pagamos entre todos esperamos que a partir de la aprobación del reglamento por parte del consejo de administración de e i te be

y que la reforma necesaria que tendrá que venir por supuesto la próxima legislatura consolide esta figura
y la adapte a los nuevos tiempos muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna

de nuestras vidas una transaccional que cambiará la historia de e i te be algo extraordinario

de este parlamento y eso que no trabajamos todos tanto como el señor iturrate pero sí debatimos lo mismo que debatimos hace cinco años y hoy se enarbola como éxito que al menos los ciudadanos vascos puedan saber

del e i te be en fin nosotros evidentemente

a la raíz de los problemas que tiene e i te be y por esto no hemos querido ni siquiera hablar de la cuestión sino plantear lo que creo que es una exigencia fundamental desde luego urgente como es la reforma de e i te be la reforma integral de e i te be está bien que se plantee

pero creo que en fin hemos evidenciado también con esta iniciativa y con esta transaccional que ustedes han firmado que prácticamente damos por finalizada una legislatura perdida para promover la reforma integral de e i te be por esto esta

que no sirve básicamente para nada y yo que respeto profundamente este parlamento

debería estar para alcanzar objetivos digamos

ambiciosos aralar presentó una iniciativa

para la creación del defensor del espectador y del oyente independiente de los órganos de e i te be en febrero del año dos mil once y estamos hoy en junio de dos mil dieciséis y leo en la prensa de aquel día veintidós de febrero de dos mil once que el consejo de gobierno del partido socialista en su reunión de hoy ha adoptado esta al entender que la actual ley garantiza tanto la independencia como la representación de los intereses de la ciudadanía a través de sus representantes parlamentarios es decir el gobierno

por aralar a juicio del gobierno vasco la defensa de estos intereses la ejerce la presidencia del consejo de administración de este ente que está nombrado por la cámara vasca

tiene un carácter muy puntual por lo que se considera fíjense ustedes más conveniente

en el seno de la comisión de control de e i te be para conocer si se procede a una modificación más profunda de la ley cinco años después de aquella iniciativa

superado y en fin cuando realmente lo que deberíamos haber hecho ya y promovido tendría que haber sido la reforma integral de e i te be por eso nuestra enmienda de totalidad que lo que plantea es que este parlamento se comprometa a desarrollar de forma urgente y prioritaria

de e i te be dicha comisión especial presentará un dictamen con las conclusiones antes de finalizar el actual periodo de sesiones y en ellas se decidirá el futuro modelo

pública vasca claro ahora ciertamente ya no hay tiempo pero es que esta enmienda de totalidad la registramos el pasado día nueve de marzo de este

acordó el pasado día siete de mayo del año pasado la creación de una comisión especial que sentara las bases de la reforma de e i te be comisión que debería crearse antes del treinta y uno de diciembre de dos mil quince y que debería presentar un dictamen con las conclusiones

de dos mil dieciséis a fin de emprender las iniciativas de reforma nada de esto se ha hecho ni se puso en marcha la comisión ni nos hemos reunido

a e i te be ni nada de nada pasan las semanas pasan los meses y los asuntos que son prioritarios que son urgentes que son importantes

por cierto todo lo que tiene que ver con el reglamento de esta cámara nosotros presentamos una serie de iniciativas ciento tres

para modificar el reglamento de esta cámara pues bien la comisión de reglamento se ha reunido durante los últimos dos años y medio una sola vez

este es el bagaje parlamentario que

a los ciudadanos vascos a nosotros ciertamente nos parece lamentable por eso nosotros décimos que lo que hace falta es proceder a una reforma integral de e i te be

profesionalizarla para que pueda cumplir los objetivos de cualquier medio público de comunicación veracidad objetividad independencia pluralidad pluralismo

e i te be que hoy día sigue estando al servicio del nacionalismo del partido nacionalista vasco y del gobierno vasco por cierto hace también ya más de un año este parlamento pidió la dimisión de la directora general de e i te be nada se ha hecho en relación a esta cuestión no se ha vuelto a insistir el gobierno vasco no cumple el mandato parlamentario tampoco la directora general de e i te be uno de aquellos grupos que pidió la dimisión de la directora general de e i te be un año después presenta una iniciativa pidiendo no sé qué cosas a esa directora general

nosotros también a pesar de que el señor iturrate dice que trabajamos poco a pesar de que soy el parlamentario más activo según las estadísticas no sé si oficiales pero ciertas presentamos también una iniciativa para modificar la ley para reformar e i te be para cambiar la elección

para redimensionarla y se votó en contra también por parte del partido nacionalista vasco en fin para nosotros lo más importante

es proceder cuanto antes a reformar íntegramente despolitizarla profesionalizarla que funcione de verdad como un servicio público a día de hoy e i te be sigue estando en manos del nacionalismo vasco del gobierno del partido nacionalista vasco y también de la izquierda abertzale

defensorías del oyente esa es la mejor forma de defender al ciudadano de defender al oyente y de defender a los que vemos e i te be que sea realmente
un servicio público y de calidad en lugar de que esté al servicio de los nacionalistas vascos eskerrik asko maneiro jauna

y luego pues hay gente que efectivamente aprovecha el viaje para

pues tratar no sé de limpiar sus malas conciencias

ahora con el adalid de la reforma integral etcétera etcétera cuando yo creo que luego en la práctica mantienen una actitud que es básicamente falsa e hipócrita falsa e hipócrita

aunque fuera sucintamente efectivamente cuando ustedes gobernaron con el apoyo del partido popular tenían

señora llanos usted lo conoce bien tenían en el acuerdo de bases la idea de la reforma de la ley paralelamente teníamos una ponencia abierta

la que llevó a que esa ponencia se cerrara y en toda la legislatura anterior no procedieron a eso que ustedes tenían inscrito como idea y como propósito en el acuerdo de bases pero es que luego ya en esta legislatura pretendiendo seguir siendo los adalides de la reforma de e i te be

se aprueba la constitución de una comisión especial y ustedes que tienen la presidencia no la convoca no la convoca entonces

que vienen de antaño le podríamos añadir también efectivamente la propuesta de modificación de ley que hizo mikel basabe y que el señor maneiro

ha comentado lo que respondió el gobierno a esa propuesta entonces comprenderá usted señor unzalu que

es profundamente hipócrita es falsa y de puro postureo a partir de ahí

egun on guztioi berriro bien volvemos a hablar de e i te be por segunda vez en una semana la verdad es que hablamos más de e i te be

porque realmente hablar hablamos mucho pero verse cada vez se ve menos claro señor maneiro y al resto de intervinientes que lo han puesto encima de la mesa

al representante del partido nacionalista vasco que desde el partido popular desde el grupo popular hemos creído siempre en que era conveniente una reforma integral por eso estaba en el acuerdo de bases pero es que en la anterior legislatura era conveniente ahora es

imprescindible y le voy a decir por qué es imprescindible porque realmente en esta legislatura más que nunca se ha conseguido

que se tenía de hacer con el dinero de todos los vascos una televisión hecha por nacionalistas solo para nacionalistas como decía matiño

hecho por abertzales y después de una lucha abertzale en eso han convertido ustedes e i te be

y que nosotros ampliamos al oyente al usuario de internet

como inherente al carácter público de euskal irrati telebista es verdad que esta figura está contemplada en la ley pero yo le doy la razón

hay muchísimos vascos que no saben que esta figura existía muchísimos muchísimos y usted decía

que usted como presidente ha tenido que responder

a e i te be y se las han remitido a usted porque según la ley es usted el que debe contestar pero dudo que directamente

del espectador de e i te be pues serán los cuatro vascos que saben porque yo le aseguro qué que esta figura existe no es algo

lo mejor del mundo mundial y es verdad que estaba establecido en la ley que reglamentariamente se tenía que regular la figura que no se ha hecho hasta ahora y que en ese

se trata de una figura como se ha dicho aquí creada en distintos medios por grupos mediáticos precisamente para ofrecer la posibilidad de enviar recibir tramitar o responder quejas sugerencias propuestas

de hacer realidad ese derecho de la ciudadanía a recibir desde los medios de comunicación públicos informaciones veraces plurales independientes y también un entretenimiento digno formativo y participativo pero para ello

el que se conozca que existe esta figura posibilitar esa relación directa entre los usuarios y profesionales de e i te be para mejorar la calidad de la programación igual que en otras radios televisiones públicas el defensor deberá atender las observaciones y quejas de los usuarios siempre que se cumplan unas condiciones determinadas evidentemente y también

una valoración a quien haya establecido ese contacto creemos también que el defensor debiera estimular a la ciudadanía para hacer uso precisamente de esa crítica de esa reflexión que permita hacer un servicio público de calidad y que permita dar explicaciones de lo que se hace porque un grupo multimedia público que vela por el respeto a la ética

y corrige errores es un medio que genera confianza y en este momento en este momento no la genera buena parte de la audiencia del país vasco hoy no tiene esa confianza puesta en el grupo de e i te be y ha quedado patente aquí en la comisión del lunes todos todos incluido el partido nacionalista vasco reconocieron que es necesario una reforma integral de e i te be se ha caído el mito se ha caído el mito ya todos

reconocemos que es necesario una reforma integral de e i te be

porque no puede ser que una televisión pagada con los impuestos de todos los ciudadanos sea un medio que recoja solo las inquietudes y los intereses

tenemos una televisión que no respeta el pluralismo de la sociedad vasca una televisión sectaria en la que los intereses partidistas han sustituido a los intereses de los vascos que confunde los intereses de la sociedad vasca con los del partido que sustenta al gobierno que contrata siempre con las mismas productoras

una televisión cuyas audiencias están en caída libre y que parece no preocupar porque lo que no es recibo es que cuando en el consejo de administración se pregunten por las audiencias la directora de e i te be

de que va a hacer para mejorar las audiencias y que lo único que diga es pidan ustedes mi dimisión esa fue la única respuesta que dio eso no es propio

por eso claro que es necesario una reforma integral del modelo de e i te be como se decidió en la comisión de este lunes y probablemente en esa reforma integral

del defensor del espectador tampoco es incompatible señor maneiro siendo como es necesaria esa reforma integral de e i te be se trabaje en el consejo de administración actual en

un cauce de salida a esa figura de defensor del espectador para que sea más conocido y para que se puedan incluir o para que se puedan dirigir a ellas quejas o propuestas porque realmente el consejo de e i te be no se renovará

y por tanto es posible hasta ese momento llevar a cabo ese papel porque ya nos han dejado claro que la reforma integral de e i te be la legislatura se está acabando y no es posible parece que para presentar leyes y veo aquí a la consejera de seguridad leyes como la de la reforma

de legislatura se puede presentar y se podría incluso aprobar

para eso no da tiempo solo para algunas cosas por eso le digo que como no es

es como el decreto de los centros era nuestro primer punto del orden del día de los centros especiales de empleo que es poco menos que las tablas de la ley de moisés y que se tarda mucho en hacerse pues por lo menos ir trabajando en esta legislatura y avanzar en defensor por eso nosotros votaremos favorablemente

arrazoia emango diot es que ese es el problema es que no se ve e i te be si hablamos más de e i te be que verlo evidentemente

no va a ser la iniciativa que nos va a cambiar la vida evidentemente

ez hartu txarrera no me lo tomes a mal baina

en vez de esta iniciativa hubiéramos presentado una proposición de ley contigo no sé si estarías dispuesto a firmar con nosotros pero bueno zurekin

y maneiro ustedes coinciden hoy y muchas otras veces en dos cosas una se escuchan a ustedes mismos exclusivamente y la segunda que han coincidido hoy

el señor maneiro por no estar presente en el debate del lunes donde se habló

y usted señor uribe etxebarria porque parece que se confundió o no hizo también un acto hipócrita absolutamente diciendo que hay que hacer una

pero bueno vamos a ir a la cuestión porque ya que se dice que hay una comisión especial y no se ha convocado aquí claro cuando las cosas se dicen a medias pues no se dice toda la verdad

aparte de todo lo que ha dicho usted que se aprobó en aquel pleno hay una cosa que usted no ha mencionado y es que allí también se reclamaba que la upv hiciera un estudio

para esta reforma integral una reforma que creo que merece la pena hacerla de forma pausada y con una metodología buena bien y entonces lo que ocurre es que ese trabajo que era previo

los trabajos de la comisión especial ese trabajo previo se entregó a este parlamento en febrero

ustedes todos saben que en ese trabajo se dice que hace falta dieciocho meses para desarrollarlo por completo y ustedes deberían saber espere usted señor uribe etxebarria espere usted porque

usted debería saber que se dice que ese trabajo debe comenzar por estudios encuestas y análisis sociológicos

el lunes pasado podía haber aceptado el primer punto de mi enmienda que decía precisamente eso instar al gobierno vasco a que vaya preparando esas encuestas esos trabajos que permitan cuando se ponga la comisión especial a trabajar

y acelerar sus trabajos pero usted no sé por qué se fue a la reforma integral que le felicité y si usted en vez de decir que se realicen encuestas y activar mecanismos de participación ciudadana

prefirió firmar y votar el parlamento vasco reitera la necesidad de abordar una reforma integral de e i te be

de la radio televisión pública esto es lo que usted en vez de comenzar con los trabajos que me está achacando que nos está achacando a los socialistas que no hemos comenzado usted no quiso comenzar con esos trabajos y sin embargo

la primera vez que ustedes reconocen que

está firmado por usted señor uribe etxebarria entonces

y me dice que lo que quería firmar no es lo que pone y quería usted hacer otra pero llegar al colmo del cinismo

cínico suele ser bastante pero al colmo llegaría si me dice que lo que usted firmó no quiere decir eso

y ustedes lo que hicieron señor uribe etxebarria

a la anterior dirección de e i te be y en esta obstaculizar absolutamente cualquier paso en la dirección de reforma

poner zancadillas a los trabajos que quería hacer la anterior dirección de e i te be y obstaculizar cualquier movimiento de modernización y de
en la e i te be esa ha sido su actitud en la anterior legislatura y en esta eskerrik asko unzalu jauna mistoa

sí gracias presidenta esta transaccional es un parche cuya repercusión va a ser y por lo tanto nosotros no vamos a apoyarla vamos a

desvían la atención lo importante como decía antes es hacer todo lo posible para que cuanto antes se reforme la ley y se reforme íntegramente e i te be

la directora general de e i te be dimita tal como se le pidió hace más de un año por mayoría de este parlamento algunos de estos grupos ya se han olvidado de esta cuestión

al partido nacionalista vasco nosotros nos reiteramos en lo que dijimos hace año y medio con el resto tiene que dimitir la señora iturbe por poner a e i te be al servicio del partido nacionalista vasco y del conjunto del nacionalismo vasco insistimos por lo tanto

esta comisión especial que se creó para la reforma integral de e i te be tendría que haberse puesto en marcha antes más allá de los trabajos de la upv había un mandato parlamentario tendrían que haber planteado sus conclusiones durante el primer trimestre del año dos mil dieciséis y la realidad es que no se ha hecho objetivo por lo tanto despolitizarla

y e i te be sigue estando al servicio del nacionalismo y algunos grupos de esta cámara que tienen más de un diputado no han hecho absolutamente nada para revertir esa situación y evidentemente me estoy refiriendo al grupo socialista cuando pudo no quiso y ahora parece como que quiere y ya evidentemente

ustedes gobernaron durante cuatro años y no cambiaron básicamente nada de e i te be a pesar de que insistimos aquí a través de iniciativas para que pudiera en fin despolitizarse profesionalizarse y ejercer realmente como un servicio público y estando al servicio como está

la mala noticia no es que se vea poco sino que los pocos que la escuchan o la ven no tengan conciencia de ello esa es la mala

en nuestros planteamientos cuáles son las miserias del grupo socialista que la reforma integral de e i te be sigue estando pendiente que ustedes gobernaron durante cuatro años y no movieron un dedo para cambiar absolutamente nada que la señora iturbe sigue siendo la directora general de e i te be ustedes ese nombramiento y ya estamos viendo cuáles han sido los resultados ustedes por lo tanto son también responsables de la situación en la que nos encontramos

señor unzalu tantos años después sigue estando en manos del nacionalismo vasco enhorabuena eskerrik asko maneiro jauna

yo no califico a su persona yo califico describo sus actitudes a efectos de cortesía parlamentaria digo por lo que me ha dicho si puede rectificar pues rectifique

haciendo una pregunta un tanto retórica pero bastante real y es

o es que tenemos pronto algún tipo de elecciones y estamos en plena campaña electoral como quien dice y bueno lo dejo aquí también caer aunque sea de una manera

erakundeetan zaudetenean aplikatzen dituzue yo estoy totalmente de acuerdo señora llanos y en eso estamos en que hay que dar a conocer

parece que cuando se está avanzando en una determinada dirección pues no sé hay algún tipo de corto circuito

y de todas maneras lo que no me puede usted negar señora llanos

es que tuvieron la oportunidad de modificar la ley de e i te be en la legislatura pasada cuando ustedes gobernaban con mayoría absoluta

era una previsión del acuerdo de bases y no lo llevaron a cabo y claro no lo llevan a cabo cuando tienen la posibilidad tienen los instrumentos tienen

el salir y decir cacarear que sí que hay que reformar hay que reformar hay que reformar la ley cuando tuvieron ustedes la posibilidad no lo hicieron

comprensión y propuestas y le puedo enseñar una carpeta llena de propuestas no como la de ustedes que tiran por lo general

su propuesta estrella es introducir comisarios políticos en e i te be pero bueno vamos a hablar si quiere de un debate que no existió porque curiosamente aquí se está hablando mucho sobre un debate pero

sobre la reforma integral mire nosotros nunca nos hemos negado a abordar un análisis o una reforma de lo que haya que reformar nunca porque como podrá imaginar señor unzalu en esta cámara no es la primera vez que se plantea eso

la propia ley lo que pasa es que se hace en condiciones se hace en condiciones se estudia la ley se reforma como fue en el año ochenta y nueve y como la posterior reforma

seguimos sin ver es el clima adecuado diferénciese por tanto el fondo y la forma en el fondo ningún problema para entrar en ese debate en cuanto a la forma y hoy reitero que desde un punto de vista del clima político no es el adecuado para poder abordar una reforma de este calado en un ámbito tan importante como el de e i te be no existe porque entre otras cosas ustedes todavía tienen pendiente una explicación pública y es por qué después de depositar la confianza en la directora general actual

las razones de verdad le retiran la confianza en ese clima es imposible y mire usted la directora general aquí

en más de una ocasión ha explicado cuáles son

coyunturales por los que están viviendo el sector audiovisual y efectivamente todas las televisiones públicas en segundo lugar

un marco regulatorio del que son responsables ustedes y ustedes en madrid que han favorecido en los años a las televisiones privadas por qué si no

quitar la publicidad de televisión española por qué

los presupuestos han menguado también tiene un carácter público y queremos que siga siendo de carácter público y por tanto a la hora de programar y a la hora de realizar llevar a cabo determinados programas

el lunes se nos va a pedir pues no sé amaitzen joan el deporte femenino etcétera etcétera pero yo como alguna otra vez les comenté quiero una coherencia

su papel público y luego la exigencia de audiencias

más que coherentes leales con e i te be leales que no lo son

ha cambiado mire la casa señor unzalu no se puede empezar por el tejado comenzar señor unzalu si me atiende
que se me acaba el tiempo no se te ha acabado ya sí se me ha acabado ya

la casa por el tejado empezar que al gobierno vasco que hiciera ese tipo de encuestas

no solo es una chapuza sino que además contraviene lo que es la propia metodología propuesta por la upv ustedes no se dignaron ni en convocar una reunión siquiera para recepcionar ese informe ni para eso
ni para debatir que es lo que íbamos a hacer menos pose menos falsedad y menos hipocresía señor unzalu uribe etxebarria jauna

matizar y aclarar una cosa al señor urruzuno yo cuando he dicho que se hablaba más lo que se veía e i te be no era una crítica a la presentación de su propuesta en absoluto es decir yo considero

parece muy difícil pues que ir haciendo propuestas que vayan intentando mejorar

en su primera intervención que no es conocida que por mucho que parezca aquí que está en la cabecera de todo el mundo y todo el mundo sabe no es así señor uribe etxebarria no le ha faltado a usted en su intervención ni uno de los mitos nacionalistas

lo primero la culpa qué raro que no la tuviese madrid la culpa

de que la calidad de e i te be sea mala es del gobierno socialista y del gobierno del partido popular oiga si ustedes fueran independientes no sé a quién les iba a echar la culpa de verdad se lo digo porque lo de asumir culpas propias

y decían que no se puede empezar la casa por el tejado hombre por el tejado

pero empezarla y usted me habla de la posibilidad

sí estaba en el documento de bases y esa razón

pues provocó que se retirase la confianza por parte del partido popular al partido socialista y tuviese que convocar las elecciones claro que hubo cuestiones en ese documento de bases

usted ha cumplido le decía todos los mitos y ahora le voy a decir el siguiente de verdad que tenemos conceptos diferentes a veces entendernos es difícil

las definiciones que se dan son diferentes porque decir que ustedes tuvieron con la dirección de e i te be anterior una actitud comprensiva

de verdad mire usted la definición

porque creo que no es la que nosotros entendemos por comprensiva ustedes utilizaban todos los medios nacionalistas

como ariete contra la dirección del señor surio con unas audiencia infinitamente mejores que las que tenemos ahora el programa que más audiencia tiene es cuestionado en un blog por el propio señor anasagasti o sea y ustedes de verdad me están diciendo que tuvieron una actitud comprensiva oiga de verdad eso sí que

cinismo como poco yo le decía

está pagada con los impuestos de todos los ciudadanos y tiene que tener una mínima calidad y tiene que tener unas audiencias y se tiene que dar cuenta de unos resultados lo que no vale es decir pida mi dimisión porque por otra parte para qué sirve

porque la señora iturbe piense a mí me da igual que mi actuación

a los partidos políticos que hayan pedido en la cámara yo no me voy yo me enroco aquí y no me voy con lo cual pedir la dimisión pues la verdad la podríamos volver a pedir señor unzalu una y otra vez pero la íbamos a tener una y otra vez hasta el final porque lo de reconocer errores propios

una televisión en la que todos se sientan reflejados no solo los nacionalistas porque ustedes están convirtiendo e i te be

en la reserva espiritual del pacto de estella porque es que de verdad

cómo se hacen los programas de debate cómo se hacen los informativos pues mirando las portadas de los medios nacionalistas

una parte de los vascos no se ve reflejada en e i te be no se ve reflejada en e i te be eso sí sus impuestos sirven para pagar e i te be como los que sí se ven reflejados es necesario claro que es necesaria una reforma integral

no me haga usted falsedad lo que no ven es que no tienen los votos

eso es lo que pasa no es el clima son los votos y perdone que le diga en la siguiente más complicado se lo fiamos muchas gracias

legebiltzarkideok egun on denoi señorías traemos hoy a este parlamento nuevas medidas de impulso al gobierno tras haber analizado y evaluado algunas políticas previas en relación a los tratamientos facilitados a los colectivos de enfermos de hepatitis cien

sobre la gestión de la sanidad en las diferentes comunidades autónomas

ha concluido que en general euskadi ha aplicado en menor medidas políticas de recorte y de privatización

a la hora de analizar la oferta de los servicios sanitarios a la población enferma no ha sido igual para todos no ha sido equitativo no ha sido universal no ha sido de calidad hay un dato

si la media nacional de las comunidades autónomas el gasto por persona fue de veinticuatro coma diez euros tengan tomen referencia veinticuatro coma diez en euskadi el gasto medio fue de

clara diferencia y que del total de gasto en tratamientos para hepatitis

fue del diecisiete por ciento del total mientras que en euskadi fue del ocho coma siete todo ello todo este gasto o esta falta de gasto esta falta de compromiso con el colectivo de pacientes de hepatitis cien

a pesar de los reiterados acuerdos de los grupos parlamentarios de esta cámara claro los grupos en oposición tanto upyd como pp como eh bildu y pse hemos acordado instar al gobierno en multitud de ocasiones

el mismo servicio sanitario que se ofrece al resto de la población

universal equitativo y de calidad para todo el colectivo de enfermos como este servicio no se está ofreciendo diferentes grupos de

se han organizado y están presentando mociones en diferentes ayuntamientos para pedirles amparo porque ya saben que el ayuntamiento no es el responsable de su tratamiento y están también realizando ruedas de prensa en aquellas instituciones que les son favorables a realizar tal acción por ejemplo en el parlamento ya han hecho dos ruedas de prensa denunciando la injusta situación

destacando la máxima injusticia que se está aplicando incluso

los enfermos calificados como f cuatro que teniendo la máxima prioridad para ser atendidos y existiendo un compromiso del gobierno vasco de haber finalizado todos los tratamientos con este grupo para enero del dos mil dieciséis todavía hay un grupo que no ha sido

además estas plataformas con los datos que poseen

datos acerca del número de pacientes existentes en euskadi según el señor darpón en la comunidad autónoma vasca hay entre

enfermos diagnosticados claro que

tampoco es que se hayan realizado tratamientos con mucho más rigor pero eso no nos consuela porque en algunas comunidades efectivamente se han comportado de una forma parecida a la del gobierno vasco

los tratamientos curativos siendo el caso más llamativo el de un paciente gallego que por retraso en la oferta de la medicación falleció

a los responsables sanitarios gallegos ante los tribunales por este retraso injustificado a la hora de proporcionarle el tratamiento retraso

no tiene no trae de nuevo la instancia para que el gobierno

que como hemos dicho ya lo hemos aprobado en otras ocasiones

porque para todos los grupos de la oposición por lo menos la oferta a todos los ciudadanos de los servicios sanitarios tienen que tener carácter de

y hoy además le pedimos al gobierno vasco en nuestra iniciativa

la promoción y el diagnóstico precoz ya que estas actividades cualquiera de los que estamos en la comisión de salud

en los servicios sanitarios conocen que el mayor rendimiento a una población lo dan las actividades de prevención promoción

las más costo eficientes es decir que para el mismo costo consiguen

resultados y todas estas acciones dirigidas a la comunidad propuestas y acciones bien realizadas antes de que aparezca la enfermedad son las más adecuadas

pero que ustedes podrán seguirme perfectamente la potabilización de las aguas la potabilización de las aguas de consumo

la contaminación por minerales etcétera generaba infecciones

importante en las poblaciones los responsables no los responsables sanitarios sino los responsables políticos de esas comunidades

infraestructura que garantizaran un agua potable para el consumo humano y hoy nadie entendería que por falta de recursos se abandonara a un pueblo

por falta de recursos a tomar agua

en la línea de la defensa de proyectos programas y acciones a emprender antes de que se presente la enfermedad al igual que hacemos con otras patologías

como hemos señalado antes por todas las ventajas que ofrecen es por eso por lo que pedimos hoy

que aborde un plan de diagnóstico precoz para conocer la magnitud del programa la magnitud del problema el total de pacientes diagnosticados y pendientes de tratamiento pero también queremos saber el total de pacientes

pero todavía no enfermos no conocidos como enfermos no diagnosticados como enfermos para una vez conocida

los adecuados tratamientos en fase precoz y que de este modo se beneficien todos los pacientes o bien infectados de

para que no avance su enfermedad para que mejoremos su calidad de vida para evitar nuevos contagios de la enfermedad porque estos pacientes infectados

porque cuanto antes ofrezcamos un tratamiento de menor intensidad tendrá que ser evitaremos agravamientos evitaremos ingresos hospitalarios evitaremos los fracasos hepáticos evitaremos la necesidad de trasplantes hepático

y todo esto será bueno para el sistema sanitario público y también para cada paciente infectado el evitar que pase a paciente enfermo

en el cáncer de mama hemos elegido un sector de población que no cumple los requisitos para entrar en el programa global

a ese grupo en concreto se les incorpora también al programa es decir que además de programas de diagnóstico precoz a determinada población somos capaces de incorporar poblaciones complementarias por factores de riesgo

porque hay y todos conocemos que el desarrollo de la enfermedad tarda mucho tiempo desde que hay infección

pueden pasar muchos años hasta que se manifieste la enfermedad pues bien queremos

cuando el paciente todavía no esté enfermo pero tenga factores de riesgo se le haga diagnóstico

pedimos y así lo hemos acordado con los otros grupos que este plan venga al parlamento para conocimiento de los miembros de la comisión de salud y aportar posibles mejoras complementarias y también hemos pedido algo que es

que se forme a los médicos de atención primaria y especialistas para que puedan detectar estos factores de riesgo y facilitar de esa manera

o la incorporación al programa de diagnóstico precoz a estos colectivos de pacientes como digo que tienen factores de riesgo

que va en favor de los ciudadanos que va en favor de los enfermos y que todos podemos

propios pacientes que se han agrupado y a diferentes iniciativas que se han tomado en esta cámara

que aquí mismo en este parlamento pedimos al gobierno que trajese a la cámara en el plazo de tres meses un cronograma específico para atender a todas las personas

porque no nos cansaremos de decir que debemos conocer el número total de pacientes que existen y además

porque a día de hoy desconocemos en qué estado además se incorporan esas personas al tratamiento pero lo cierto es que el plazo ya se ha cumplido y el gobierno ha vuelto a incumplir un mandato parlamentario y está demostrado que cuando un departamento quiere el gobierno quiere viene a la comisión a presentar sus planes sus informes o sus propuestas y lo hace a petición propia en el caso de la comisión de salud lo hemos visto en más de una ocasión

no interesa lo triste es que en ese punto primero de la enmienda transaccional que hemos firmado tenemos que volver a hacer mención a la necesidad de conocer la magnitud el alcance el censo el número de personas enfermas

además ese plan de diagnóstico precoz que solicitamos al gobierno también viene recogido de una manera u otra en la segunda línea estratégica del plan para la atención de la hepatitis cien es el objetivo dos punto cuatro que habla de diseñar a medio y largo plazo

podríamos seguir hablando de las cuatro líneas que se recogen en el plan estratégico la primera no se ha cumplido la segunda tampoco y la cuarta no la conocemos

sobre los aspectos fundamentales de la hepatitis o cualquier enfermedad infecciosa ez dakigu kanpaina komunikatiboa martxan jarri den ala ez baina egia esan

para cuando al próximo gobierno le toque traer planes a esta cámara o tenga que rendir cuentas a este parlamento es posible que nos encontremos

por tanto ahora firmamos quedamos muy bien pero luego ya veremos

en multitud de ocasiones sobre este asunto pero las veces que hemos debatido sobre esta materia en este

de la puesta en marcha de los nuevos tratamientos de la hepatitis

y retraso también sobre todo teniendo en cuenta que se elaboró un plan estratégico para el abordaje de la hepatitis cien nacional impulsada por el

alonso que era el paraguas inicial para que luego las comunidades autónomas

estrategias como sucedió con la propia estrategia vasca la estrategia

realizada por el doctor rodés una de las principales autoridades en hepatología en españa y en ese comité estuvo presente también

de la comunidad autónoma del país vasco por cierto esa estrategia además fue aprobada por unanimidad en el consejo interterritorial y hay que recordar

que españa además ha sido uno de los países pioneros en incorporar los medicamentos estos medicamentos de última generación que sin duda han abierto una puerta a la esperanza a muchos enfermos de hepatitis cien y desde luego

de curarse y de mejorar su calidad de vida pero como han señalado

y otras comunidades autónomas nos han sacado ventaja en la aplicación de estos nuevos tratamientos que incluso ha llevado a decir y que por parte de ese grupo hayamos denunciado en varias ocasiones y a propósito de los debates sustanciados la discriminación que sufrían los enfermos

respecto a pacientes de otras comunidades autónomas hoy debatimos una cuestión más tangencial con la hepatitis cien que es la elaboración de un plan precoz

para su diagnóstico precoz nosotros estamos de acuerdo en la iniciativa

que tiene un lugar específico en el plan estratégico para el abordaje

y una de ellas es la prevención constituye una de estas líneas estratégicas y cuando se habla de la prevención en esta estrategia nacional

prevención en el ámbito primario la prevención primaria para reducir la incidencia de la hepatitis cien la prevención secundaria promover el diagnóstico en poblaciones prioritarias y la prevención terciaria prevenir la mortalidad y complicaciones derivadas de una infección crónica

por lo tanto consideramos pertinente que se incorporara una referencia específica

y así los grupos que han impulsado el acuerdo lo han considerado oportuno y por lo tanto nosotros dado que se ha incluido esta cuestión

en la elaboración de este plan de detección precoz votaremos a favor como se decía aquí por parte de la señora roncal

en un estado precoz de las distintas enfermedades sobre todo para poder mejorar la calidad de vida de los enfermos evitar agravamientos y evitar la mortalidad en esta comunidad autónoma

distintos programas de detección precoz de algunas enfermedades sobre todo algunos que tienen que ver con enfermedades son programas que tienen su éxito no obstante también hay que impulsar acciones como lo hicimos la semana pasada encargando un estudio también al gobierno vasco para llegar con los programas de detección precoz de cáncer de mama a aquellos colectivos que tienen mayores dificultades o aquellas zonas también en donde tienen una mayor dificultad

el acceso marca también la equidad que es uno de los principios que debe regir la actuación sanitaria por lo tanto creo que el acuerdo es oportuno y bueno esperemos que esta vez el gobierno sea diligente y no tengamos

próximamente ya sería en la próxima legislatura una iniciativa de estas características ya con el gobierno obviamente que esté configurado pero

un poco infructuoso para la labor de esta cámara en materia legislativa ver

en donde sí que hay que decir de forma muy clara que esta vez no hemos sido pioneros besterik gabe

elkartasuna arreta sanitarioaren kalitatea eta herritarren parte hartzea por todo ello se hizo necesaria la puesta en marcha de una estrategia para la atención de la hepatitis cien en euskadi que articulase

la organización y la financiación de los recursos del sistema sanitario de euskadi a la vez de realizar una evaluación periódica y permanente de los resultados en términos de salud de las personas afectadas para promover planificar y coordinar las acciones

y todo ello con el fin de garantizar la atención adecuada a las personas afectadas por la hepatitis cien

esta estrategia se articula fundamentalmente en cuatro líneas de actuación

en cuanto a su estructura operativa la estrategia se fundamenta en tres comités el comité director el comité clínico asistencial y el comité social y de participación ciudadana

por la falta de información epidemiológica contrastada por otra parte muchos de los aspectos referidos a la terapia antiviral están cambiando constantemente

y a medida que se van obteniendo nuevos datos o se producen cambios en la situación

creo que alguna portavoz a confundido

continua y los nuevos datos y las actualización con incumplimientos

en nuestro entorno su trasmisión ha estado ligada fundamentalmente al medio sanitario

y a consumo de sustancias por vía intravenosa mayoritariamente en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado más raramente la trasmisión se pude producir en profesionales sanitarios por deposición accidental a sangre transmisión materno fetal o relaciones sexuales con presencia de sangre como decía a pesar de no disponer de información epidemiológica constatada

era necesario en origen partir de un escenario determinado como punto de partida para poco a poco irlo aproximando a la realidad a la prevalencia de la para conseguir la auténtica prevalencia de la infección

desde que a comienzos de los dos mil aparecieron los primeros tratamientos eficaces

garantizado la terapia más adecuada a todas las personas con hepatitis cien crónica en base a criterios médicos

hay algunos hitos a partir de ese momento fundamentalmente en dos mil once en que aparecen los primero antivirales de los de primera generación y en dos mil catorce un granito con los nuevos

como en el resto de países de nuestro entorno en euskadi hay varios miles de personas con esta enfermedad aunque con distinto grado de daño hepático todas las y los pacientes

monoinfectados o coinfectados con el vih son considerados candidatos

debido a la imposibilidad de realizar este tratamiento a todas las y los pacientes en un corto periodo de tiempo

el plan de actuación terapéutico se ha elaborado conjuntamente con los especialistas de osakidetza que atienden

en línea con los criterios establecidos como aquí se ha recordado por el comité de expertos del ministerio de sanidad sí me gustaría con carácter general

en el concreto debate de esta cuestión hablar como se ha hablado ya de algunos datos y tiempos datos y tiempos que en ningún caso pongo en duda y creo que nadie los ponga datos y tiempos que hablan de ser pioneros y datos y tiempos

que hablan de auténtica diligencia del gobierno dos mil catorce dos mil catorce antes de la autorización para uso comercial de los nuevos antivirales son muy sencillos además antes de la autorización para el uso comercial de los nuevos antivirales

en dos mil quince una vez autorizados los antivirales osakidetza ha tratado a otras mil quinientos treinta y tres personas en bi mila hamabost mila bostehun eta hogeita hamairu y a datos de dieciséis de mayo

en dos mil dieciséis ya se han tratado a otras setecientos noventa y nueve personas afectadas por esta enfermedad es decir

personas aproximadamente tratadas con los nuevos antivirales en

no llegamos a año y medio cuando el plazo marcado que aquí también se ha recordado por

por el grupo de expertos liderado por el doctor rodés hablaba de tres años vamos muy por delante de ese plazo vamos muy por delante de otras comunidades vamos a un ritmo de incremento de ciento ochenta pacientes nuevos en tratamiento al mes

a permitir alcanzar los objetivos planteados en la estrategia

de lo previsto tratar a todas las personas además esos objetivos en genérico consiste en tratar a todas las personas afectadas por esta enfermedad con absoluta normalidad

atendiendo a criterios médicos y de equidad como se está haciendo me centraré ahora en las líneas estratégicas de actuación líneas estratégicas líneas estratégicas que se aprobaron por orden de catorce de julio del dos mil quince

y estrategia que tiene hoy menos de un año desde su aprobación que vemos que se está cumpliendo ampliamente con estos datos

primero determinar la magnitud de la infección por el virus de la hepatitis cien y la hepatitis cien crónica segundo medidas preventivas tercero definir el plan de actuación terapéutico y cuarto

como ya se ha dicho de estas cuatro líneas de actuación el debate que hoy afrontamos se centra en la primera línea estratégica determinar

de las y los pacientes para ello es necesario conocer el número de personas infectadas las nuevas infecciones

de la enfermedad estos son los objetivos específicos de esta línea y para alcanzar estos objetivos se están realizando concretas acciones que plantea la estrategia una revisión de los datos disponibles en la actualidad sobre las personas infectadas por el

en consulta y aquellas que inician tratamiento estas acciones de la

por el partido socialista y a decir verdad no distaba mucho de él

una diferencia era más bien formal al recoger en nuestro caso

a nuestra estrategia la enmienda del partido popular partía de una base similar si bien formalmente hacía referencia a la cuantificación de la magnitud del problema recogida en su referencia al plan estratégico del

por todo ello ha sido relativamente fácil como se ha comentado llegar a un acuerdo en el núcleo de esta cuestión recogido en el punto primero del texto transado

como han comentado la portavoz de eh bildu presentarlo en la comisión de salud cuestión que es práctica habitual del departamento y por todos reconocida y la aportación

de los profesionales en la atención primaria cuestión que ya se está haciendo

y que además recoge o nace con un amplio consenso y una colaboración entre los grupos eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna

señora presidenta si me lo permite desde el escaño que el dato de la magnitud si se lleva un año trabajando

no hemos llegado a conocerlo porque efectivamente

conocer la magnitud del problema como siempre aquí hablamos de todo lo que se hace pero nos queda en cartera la parte negativa cuánto falta de lo que no se hace cuánto falta para alcanzar el total

ya sabemos que el departamento hace su esfuerzo ya sabemos que pone tratamiento para los pacientes

lo que no sabemos no hemos conseguido saber en todo este tiempo es

qué esfuerzo económico le va a suponer eso y qué esfuerzo temporal

le décimos que lo haga que tiene el mandato para hacerlo y que nos lo tiene que hacer programado y con los recursos adecuados a esa programación

las gracias a todos los portavoces porque efectivamente ha sido

muy fácil y muy agradable haber logrado un acuerdo nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal andrea eztabaida amaituta